eta bereziki erantzun eraginkorren premiari buruz gogoeta batzuk como comentaba vamos a empezar con una consideración sobre el instrumento

un instrumento de democracia semidirecta y que consideramos que merece una toma en consideración por parte de esta cámara al menos un no menosprecio

criterio desfavorable nos plantean una ley futura de la que aún no hay anteproyecto y que además

represento que no se contradice con nuestra iniciativa en ese sentido sí que queríamos hacer un emplazamiento lo han estado haciendo las asociaciones que forman parte de esta plataforma los últimos días la federación del ampa de la escuela pública

de la escuela pública hacemos un emplazamiento a que se debata y se aborde este tema que luego si llega a tiempo la ley si la ley consigue llegar a tiempos perfectamente hemos visto que hay otras ilp que así se han tramitado puede subsumirse esos artículos se pueden integrar

se podrían tomar unas medidas urgentes que luego ya posteriormente se podrían integrar en futuras leyes

en ese sentido sí quería destacar que junto con el portazo hemos detectado lo que consideramos que es una trampa en el procedimiento que no existe por cierto de manera tan agravada en otras normativas hemos estado mirando el parlament de cataluña hemos estado mirando en el congreso en madrid

que se viene a este parlamento se cumple con los requisitos sabiendo que nuestro papel es el de traer un debate y el de ustedes decidir

pero claro nos encontramos con este último traspiés

cuando ya habíamos cumplido todos los requisitos y con esto

la experiencia de la participación ciudadana en una institución como el parlamento diciendo que aunque en general animamos

visto lo anunciado pues diríamos ojo con asomarse

tiene su riesgo la segunda consideración es sobre el tema de la gravedad y la urgencia del propio tema de la segregación escolar

gardentasuna nolabait falta ezta el propio fenómeno de la segregación escolar y ese es un tema clave a la hora de plantear medidas muy concretas

es un fenómeno que es como una moneda de dos caras

de alumnos con dificultades y necesidades de apoyo en unos centros

hay una exclusión de ese alumnado en otros centros en su versión extrema hay unos centros que son centros gueto y otros centros que son centros búnker donde no entran ese alumnado con discapacidades con necesidades socio económicas becados con incorporación tardía al sistema educativo

este diagnóstico de qué problema cuál es la dimensión del problema básicamente

en el gueto es un trajimos un especialista de cataluña que citaba a una socióloga francesa

el derecho a la educación básicamente qué es es tener unas mejores canchas de futbol dentro de unos márgenes el profesorado es importante pero dentro de unos márgenes tampoco hay unas diferencias enormes como media en distintos centros

la escuela son sobre todo los alumnos que van contigo a la escuela esos son fundamentales y en ese sentido acumular en determinados centros a todos aquellos que tienen mayores dificultades

que está violando el derecho vulnerando el derecho a la educación

eta hori da hori da gure enfokea ezta actuar sobre esas barreras esas barreras que están condenando a unos alumnos a un tipo de centros y que impiden que entren en otros son barreras de tipo tangibles y también intangibles hay todo tipo no todos son motivos económicos

uno de los ejes que es el planteamiento que hacemos y sabemos que no es el único el eje de escuela pública gratuita versus concertada con copago sabemos que no es el último eje hay otras y por eso hay otras medidas que no solo afectan a las cuotas

es clarísimo les animo a que se hagan algunas encuestas de opinión y tal hay un desconocimiento total sobre el régimen legal y sobre la gratuidad de ese servicio

por eso hay propuestas ahí de transparencia de control y que tiene una especial trascendencia siendo la mayor red concertada de toda europa la que tenemos junto con flandes pero no nuestra situación educativa no tiene comparación con el sistema francés o el sistema alemán o el inglés en cuanto

claro ese problema del copago tiene una enorme dimensión porque afecta a la mitad de la red

tenemos una hipótesis me voy a atrever tenemos

se dice no a este debate creemos que ya ha pasado la fase denegación y estamos

hay propuestas que solo quieren ir a los cuidados paliativos

pero hay otras medidas que lo que plantean es romper los enormes desequilibrios que hay entonces

afectar también a su realidad y esa es la clave creemos que ese es uno de los problemas sobre las medidas porque citaba el tema de las cuotas claro ese tipo de medidas que afectan al equilibrio al gran desequilibrio entre redes tienen grandes repercusiones las cuotas

que necesitarían para cumplir la gratuidad que marca la ley necesitarían un veinticinco por ciento más de financiación eso es lo que han planteado desde

porque no está en cuestión el concierto a través de encargar la gestión de servicio público a unas entidades

lo que está en cuestión en esta iniciativa es en qué condiciones se está concertando ese servicio

servicio que no es sostenible con ese copago con esa desinformación total sobre su gratuidad

y no atendiendo a una diversidad que las propias normas la atención a esa diversidad

de dinero público sabemos que a parte de los temas económicos hay un tema de miedos lo hemos comprobado en la campaña la aporafobia esa fobia un poco a los problemas relacionados con la pobreza sabemos que eso también existe y sabemos hemos detectado

hay gente que ante esta reacciona un poco desconcertada vaya lio

y hay una tentación de hacer el avestruz pero no somos ingenuos también sabemos que ya es consciente la situación y no tiene ninguna intención de que se quiten esas barreras esas barreras que impiden que una serie un tipo de alumnado

así las cosas queríamos terminar con un emplazamiento

que habían planteado dudas sobre la idoneidad de nuestra iniciativa

simplemente les pediremos que actúen con coherencia con

mantener este status quo con parches ineficaces sin abordar medidas

desequilibrios estructurales tiene ganadores y tiene perdedores tiene privilegiados

les pedimos que no se enroquen negando este debate que hemos traído aquí estas propuestas que hemos traído un veto hoy a este debate creemos que prolongará las barreras y los mecanismos segregadores que existen en nuestro sistema educativo solo hay que ver los resultados la realidad

con escuelas para pobres y con centros bunker donde no son atendidos

una hora que puede ser recordada de dos maneras cuando acabe este debate

que abra sus puertas y posibilite la participación ciudadana que abra las puertas al debate ciudadano y a las propuestas que desde la ciudadanía directamente tiene derecho a traer y que se tomen en consideración este parlamento o por el contrario puede pasar otra cosa

que han apoyado la primera ilp de esta legislatura y con la nueva metodología veremos

y me da pena la verdad lo que puede pasar lo que se ha anunciado

suscribir palabra por palabra punto por punto las palabras de

y sentarme y ya estaría suficientemente explicado baina elkarrekin podemosetik gure babesa eman genion ekimenari

la ilp son medidas sencillas rápidas

en algunos casos pero que son medidas que merecen ser debatidas son medidas irakaskuntza doan eskatzen dute

ikastetxeekin por qué dar más privilegios a los privilegiados por qué dar más ventajas a los aventajados y por qué no hacer discriminación positiva como propone

a los aventajados decía que la iniciativa es clara

no voy a decir que no es complejo su puesta

busca es un sistema educativo vasco equitativo e inclusivo son medidas sencillas y viables como ha explicado el señor

privilegios fomentar la cohesión social fomentar la diversidad la diversidad que por otra parte existe por mucho que algunos y algunas no lo quieran ver y diversidad que no sobra sino que enriquece sin embargo

en las presentaciones en los debates que tenemos en los dos últimos años y antes en este parlamento que no todos los grupos parlamentarios

hasta normal pero estamos hablando de la cohesión social del sistema educativo que eso quiere decir de la cohesión social de nuestra sociedad

y creo que se ha dicho ya que el partido nacionalista vasco

lo mismo ya se ha mencionado el espíritu democristiano que pueden tener ambos partidos el espíritu liberal

ese espíritu que vemos en su modelo educativo pero yo creo que hay que hacer preguntas de hoy hay que hacer preguntas lo siento les toca a ustedes señores y señoras del partido socialista qué ha pasado qué ha pasado en estas semanas qué ha pasado para que eh bildu elkarrekin podemos

popular desde el primer día con sinceridad

sorpresas no sabemos si el partido socialista va a dejar de lado la ilp o la

qué precio tiene dar la espalda a esta iniciativa por la equidad en la escuela yo sinceramente y además se lo digo de corazón no lo entiendo señor pastor no sé qué nos contará después no sé qué es lo que yo creo que más les debería de preocupar qué le contarán a sus electores

o esta puerta atrás mejor dicho a esta ilp

un síntoma del nuevo tiempo político espero que así no lo sea

representante de la ilp ha explicado claramente cuáles son los motivos que justifican la toma en consideración de la ilp y qué medidas se proponen no vamos a repetirlas de nuevo pero sí que quiero traer tres datos a esta cámara que creo que ayudan que ilustran

que no lee las estadísticas y que no se pasa por las escuelas segregadas por los guetos que hablaba

es la comunidad autónoma o región de toda europa que más educación privada subvencionada tiene la media europea de la educación pública es más del ochenta por ciento aquí el cincuenta por ciento o sí no toquen la puerta en navarra toquen la puerta en iparralde y miren

se nos tendría que caer la cara de vergüenza dos en los últimos diez años el índice de segregación escolar por criterios socioeconómicos es decir por criterios no solo por criterios de clase ha aumentado casi un nueve por ciento en euskadi y tercero la escuela pública

educativo y lo hace con los mismos o con menos medios que otro tipo de educación y la ilp lo ha explicado sabin zubiri en esta tribuna no iba tampoco

hacia la eliminación de los conciertos lo que estaba buscando es la equidad que se pueda incluso en vuestra terminología competir en igualdad

tres realidades que su gobierno se niega a asumir se niega a reconocer y lo que es más grave se niega a actuar sobre ellos y preparando esta intervención yo les iba a decir bueno abran los ojos de una vez pero es que yo creo

bien abiertos que no hacen caso ni a lo que dice el ararteko ni a lo que dice el consejo escolar de euskadi ni a lo que dice

a lo que dice la comunidad educativa y me apena me apena que no hagan caso pero me apena darme cuenta

de no haberme dado cuenta que es que es su modelo este modelo segregador este modelo segregador por redes segregador por clase y segregador por origen es el modelo que ustedes están defendiendo

porque el modelo educativo de euskadi no es equitativo no es inclusivo y si es excelente lo es porque tiene una comunidad educativa luchadora

mirar un poco los argumentos del gobierno del criterio

bastante baratas dicen que hay una

no sabemos si va a venir un anteproyecto vendrá no lo sabemos hezkuntza lege berria martxan dagoela diozue

mentira comunicado de alguno de los sindicatos

salatzen dute eragile hauek no pongáis parapetos de la parte social porque no tenéis

no son palabras mías son palabras de ellos mismos que ellos tienen sus propios portavoces para hacerlo pero tampoco necesitan y tampoco necesitamos que pongáis escusa que pongan escusas fáciles baratas y que se rebaten fácilmente a esta

así una vez más asistimos pues no sé a un cierto teatro del gobierno un gobierno que vemos aquí vemos las grandes intervenciones los grandes papeles y vemos si el gobierno tan participativo

tan bien común que viene una ilp y puerta a la calle sin debatir sin tramitar esto si es auzolana si es bien común y es participación democrática vaya tela vaya tela

pero no perdemos la esperanza la verdad no perdemos

alguien recapacite y lo digo de nuevo mirándoles a ustedes señores y señoras del partido socialista

pero entonces qué ha cambiado qué ha cambiado señores del partido socialista de euskadi en estas semanas espero que en estos minutos haya tiempo de cambiar de nuevo sabemos que estuvisteis como decía en esas ruedas de prensa porque creíais en estas propuestas incluso a veces llegamos a acuerdos en la comisión de educación

de ley lo digo sinceramente pero no sé lo que ha cambiado

en estas semanas lo único que espero por el bien de la democracia

que tenemos que dar trámite en el día de hoy que apoyéis esa ilp del pnv y del pp no espero nada eh bildu sé lo que va a hacer nosotros y nosotras sabemos lo que vamos a hacer solo quedan ustedes para que esta ilp salga

neurriak jartzea lo hacemos por debatir lo hacemos por acabar también con la segregación escolar en euskadi y estamos dispuestos y dispuestas a llegar
a acuerdos en esa tramitación que se haga de esta ilp ojalá que se haga eskerrik asko eskerrik asko

señoras y señores miembros del gobierno lehendakari miembros del gobierno señoras y señores parlamentarios el grupo popular

a la tramitación de esta ilp y permítanme explicarles por qué en nuestra opinión con todo el respeto respeto que a veces a nuestro grupo

en alguna recomendación que le ha hecho el pnv el proponente pero nosotros sí respetamos a todo el mundo en nuestra opinión

esta iniciativa legislativa popular no debe ser debatida porque

centra el problema de la educación donde debe centrarla que es en nuestra opinión en la financiación ese es un problema que tampoco creo que se esté abordando

el primer artículo de la ilp lo primero que nos

la gratuidad de la enseñanza será observada en todos los centros sostenidos con fondos públicos de forma que el departamento responsable en materia educativa velará para que sea erradica toda práctica abierto o encubierta

desarrollando los mecanismos de control este artículo uno está imposibilitando la elección que hacen en estos momentos más de la mitad

más de la mitad no casi la mitad de las familias del país vasco es un artículo que enfrenta a la comunidad vasca no es con este tipo de declaraciones de leyes y de artículos como se va vamos a conseguir tener una comunidad educativa cohesionada

e inclusiva no no es dando un barriendo de un plumazo casi a la mitad de la comunidad educativa

se ha presentado hace muy poco el informe del consejo escolar vasco y la presidenta nos decía hará dos o tres días que hay que hacer una ley educativa sí pero una ley que no vaya contra nadie

y una ley que tenga vocación de permanecer en el tiempo y nos habló de cosas muy interesantes que hay que abordar antes de hacer una ley que vaya contra la mitad de las familias porque eso es lo que hace

nos dijo que el sistema educativo recibe un gran input es decir una gran cantidad de recursos más recursos que ninguna otra autonomía española

los resultados son pobres pobres

y entonces dónde puso ella el problema el problema lo puso en ese medio

en el sistema escolar y habló de evaluaciones internas de cada centro y todo eso es lo que tenemos que resolver antes de decir

educativo vasco tiene problemas y la culpa de todo la tiene la parte concertada y por lo tanto lo que hay que hacer es quitarle recursos no no se puede enfocar así los problemas

de financiación eso no quiere decir que no haya partes de esta iniciativa que por supuesto respetamos

nos parece muy interesante ahora bien no colectivo individual

el eje del sistema educativo debe ser la persona la alumna y el alumno y nosotros cogemos esta sugerencia de esta ley

en futuros debates y en futuras intervenciones entonces por eso porque creemos que el gran problema de la educación en euskadi es la financiación equitativa la financiación equitativa poner al alumno en el eje

y creemos que esta es la forma de conseguir la equidad y no creemos que esta iniciativa legislativa lo haga sino al contrario creemos que enfrenta

a la comunidad vasca entre sí a la comunidad escolar vasca entre sí lo último que querríamos que sucediera muchas gracias

socialista considera que el debate sobre la escuela inclusiva sobre la escuela pública inclusiva para evitar que haya una educación a dos velocidades debe ser abordado por esta cámara

y compartíamos por eso el criterio inicial del gobierno que era favorable a la tramitación de esa iniciativa pero compartimos también con el gobierno que el ámbito para afrontar esta cuestión

todo lo que afecta a la formación con el eje de la escuela pública y compartimos con el gobierno que existen los mimbres para afrontar las cuestiones a las que se refiere

que como ustedes han recordado los socialistas hemos acompañado desde el primer momento y esos mimbres están en los planes en marcha para corregir la segregación

en algo que nos importa mucho que es el pacto educativo que se alcanzó hace unos meses y ese pacto para nosotros es muy importante porque ha sido un punto de inflexión entre la relación entre el departamento y la comunidad educativa y como destacamos nosotros en el pleno de política general creo que en exclusiva todos los agentes que lo han hecho posible merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento pero nuestro objetivo es ampliar ese pacto y contábamos con poder hacerlo para que la ley de educación

no se demore y de hecho teníamos prevista una discusión y una votación

porque la presidenta de la comisión ha decidido posponer este contraste entre los grupos para incorporar aportaciones de todos es una tarea pendiente y que va a estar seguro

que vamos a dedicar a la comisión dentro de un par de semanas por eso mi grupo cree que los promotores de esta iniciativa

como una derrota porque no lo es como sabemos bien los grupos parlamentarios y los distintos gobiernos las propuestas legislativas que traemos unos u otros

o son sustancialmente modificadas después pero eso no es ninguna derrota el esfuerzo realizado el trabajo de estos meses

y ha conseguido poner en la agenda definitivamente la necesidad de abordar las reformas educativas con esa visión inclusiva en todos los aspectos y con la escuela pública como eje desde luego los socialistas queremos estar presentes en los debates que nos esperan y la realidad de nuestros centros educativos de sus carencias y de sus virtudes en nuestro trabajo hace casi tres décadas pusimos los cimientos de la escuela pública la que supo integrar a las ikastolas y que ha ofrecido un modelo sólido y de calidad un modelo que debemos revisar ahora con otro gran pacto que diseñe la escuela pública para al menos el mismo tiempo para que la enseñanza no esté sometida a los vaivenes de las coyunturas políticas y queremos pensar que más allá de las diferencias que se han manifestado en esta sesión

existe porque es así una amplísima conciencia compartida de que nuestras aulas deben ser un anticipo de la sociedad que queremos

para ello debe contar con los recursos necesarios con la preparación y motivación de los docentes

y con un consenso social y político básico la educación y la sanidad son las primeras puertas para corregir la desigualdad

o tenga los ingresos que tenga deben ser atendidos sin distinción nos jugamos

si no somos capaces de corregir a tiempo las disfunciones que nos vamos encontrando o si dejamos arrinconados a quienes presentan dificultades añadidas para su formación eso es lo que está en el fondo de esta iniciativa que nos ha traído hasta aquí zubiak eraikiz

y está también en el motor que debe impulsar la nueva ley de educación el grupo socialista

de construir una escuela pública inclusiva y proyectada desde el siglo veintiuno en la que nadie
debe quedar arrinconado muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

legítimamente ha hecho una propuesta pero tan legítimo como hacer una propuesta es discrepar con la misma por entender que no es adecuada compartimos el objetivo pero no el instrumento propuesto a pesar de la discrepancia respetamos la opinión de las diecisiete mil personas firmantes por eso mismo exigimos respeto

que nos han votado libre y conscientemente en base a un programa

gracias señora presidenta buenos días compañeros parlamentarios parlamentarias argentinara joango gara hilabete eskas barru hemengo

podemos decir desde lo curioso a lo extraordinario a mí personalmente lo que más me impactó la primera vez que fui

en un euskera fluido para que luego digan que es difícil argentinara y es extraordinario también ver cómo han conservado sus costumbres bueno nuestras costumbres

como una especie en un acto de amor a su propia cultura a su identidad yo creo que en un acto de dignidad personal y colectiva también

nietos biznietas de quienes tuvieron que marchar de euskal herria para refugiarse de la guerra del franquismo o de la miseria sin más por eso de la semana vasca además de la fiesta lo más bonito o lo mejor es

tiene una historia pues como la de una mujer no mucho mayor que yo

a argentina en barco con su madre y casi murió deshidratada en el viaje

sus cuatro hijos estudian en la universidad y hablan euskera son parte de una comunidad la comunidad vasca en el exterior que describe así la euskaldun de uruguay gloria zuazola gloria dice pertenezco a la diáspora

adelante y bebiendo hasta el pasaje como decía mi padre la que llegó a trabajar honestamente

y ayudar a construir aportando y recibiendo valores sin olvidar sus costumbres y tradiciones

pero aprendiendo también a querer a la otra patria que le abrió sus puertas educando a su descendencia

trabajo y solidaridad esa es su diáspora la nuestra también la de las descendientes de migrantes

la de personas que tuvieron que dejar su tierra para poder vivir mejor o simplemente para poder vivir

porque nos ayuda a comprender mejor otras realidades como

ofrecer cualquier techo acoger es atender es escuchar es acompañar

tener que buscar refugio en otro país dice ana gabriel que cuando te marchas lejos de casa encuentras muy importante todas las muestras de solidaridad que te llegan

que te ofrece ayuda la gente que te hace sentir que te abre las manos y que está allí

voy a tomar prestada la metáfora de un compañero que compara el sistema vasco de servicios sociales

los arquitectos navales diseñaron una buena embarcación pero en los astilleros decidieron no hacer caso a los planos y así cuando el barco ha tenido que afrontar

ha hecho aguas utilizar las bombas de achique solo permite ganar tiempo no queda más remedio que regresar a puerto

cuando ha llegado el temporal hemos visto que el sistema vasco de servicios sociales hace aguas se han improvisado parches pero esto no funciona horregatik uste dugu horregatik uste dugu

no seamos ilusas en la ilusión de seguridad podemos pensar que los muros se hacen para protegernos

no se hacen para eso se hacen para desproteger a los otros y a las otras a los que quedan al otro lado y a los que por estar al otro lado les despojamos del ser de la calidad de personas esas no personas están esperando a las puertas de los muros y las vallas y hay algunas a las que sí dejamos pasar les dejamos pasar porque para que nosotras sigamos siendo personas

su fuerza de trabajo les dejamos pasar como objetos de consumo porque no nos engañemos los muros construyen esclavitud alimentan grandes crímenes internacionales como el tráfico de órganos o la trata de seres humanos hay algunas dice maleno

a las que la matriz define como violentas como hordas que asaltan como enemigas y eso nos da la excusa

y convertir esos espacios alrededor de muros y vallas en zonas de conflicto y de guerra y mientras las europeas y los europeos seguimos conectados a la matriz de la seguridad

gestionando una realidad que no es real al otro lado las no personas se debaten en un laberinto de trampas mortales para poder atravesar los muros las vallas y los mares pero no les vemos porque esa es otra función del muro

no nos deja ver lo que hacemos a los otros y a las otras nos hace sentir seguras de que somos buenas y somos acogedoras pero todos aquellos a los que la matriz

también tienen historias historias que explican cómo llegaron al otro lado que explican por qué están aquí porque al otro lado late un gran instinto de supervivencia que busca llaves claves para saltar esas vallas y esos muros

nos creemos y algún día puede decir que somos las enemigas que somos buenas esclavas que somos cosas que no somos personas y que por lo tanto tenemos que estar al otro lado del muro mi regalo decía helena maleno son las llaves que abren las puertas de los muros y de las vallas más que un regalo es un aprendizaje por si algún día lo necesitamos

porque esto es de lo que va esta proposición de ley como ya he dicho muchas veces en esta cámara euskadi es una tierra de tránsito y debe de ser desde luego una tierra de acogida

en tierras más al norte a los que les ofrecemos tres o cinco días en un camastro de emergencia

por las niñas y los niños que también vienen hasta aquí y a los que hacinamos en centros

que se sientan bienvenidas también por las miles de mujeres y niñas tratadas que pasan por bilbao como un punto caliente en la trata de seres humanos mujeres y niñas que se nos escapan

estamos detectando por las personas que están en el entorno del puerto que no se han ido ni han desaparecido y a las que les quitamos las tiendas para que no hagan feo

la precariedad y el abandono institucional así como por todas las que sufren racismo y xenofobia con base al miedo la precariedad o simplemente porque hay quienes ven en el racismo una oportunidad para rascar votos a costa de lo que sea

guste más o de menos a este gobierno reconocerlo se estima que puede haber más de setenta personas durmiendo

entre ochenta y ciento treinta personas que han sido acogidas de forma solidaria por la ciudadanía organizada en bilbao muchas más acogidas por la solidaridad anónima entre ochenta y ciento treinta personas estables en los últimos meses a quienes este gobierno no ha sabido o no ha querido escuchar hasta después de presentar su programa de buenas intenciones

hablan pareciera que están haciendo el camino de santiago y nada más lejos de la realidad

a francia normalmente tras años de cruzar desiertos estafas hambre pobreza

muchos abusos los que tienen la suerte de llegar están cansados lastimados y muchos tal vez necesiten parar es nuestro deber

no lo creo es nuestro deber no hacerles sentir bienvenidos para que no se queden desde luego que no tenemos que ser capaces de informar y ofrecer el compromiso pero a ellas compromiso con su vida no con la supervivencia con sus derechos no con limosnas con su futuro

ezinbestekoak izan dira pero nuestra labor no es la de venir a decir lo bien que lo hacen sino la de controlar y proponer donde vemos que hay márgenes de mejora y aunque es verdad que este gobierno asume que lo que están haciendo ni es perfecto ni suficiente

lan egin dugu porque la llamada adecuación de la estrategia del gobierno vasco para una respuesta integral ante los nuevos retos migratorios que se ha publicado y que conocemos

dice querer ser integral pero está lejos de ser suficiente para el reto que tenemos por delante por un lado porque las buenas intensiones y la confianza en el gobierno del estado o en el de europa no garantizan una acogida adecuada aquí y ahora

la migración como un problema cuestión que dificulta encontrar soluciones estructurales no es la primera vez que euskadi se enfrenta a procesos migratorios masivos

en esta propuesta la intención del gobierno parece buena pero ha de concretarse en buenas acciones para que no se quede en una mera declaración de intenciones

la iniciativa de los corredores humanitarios para acoger a niños que estuvieran solos iniciativa compleja y bien intencionada que se ha vendido a la prensa como en cuatro ocasiones pero que ha quedado en nada cero no hay avances y mientras tanto los niños aquí en centros con una clara y sistemática falta de plazas

pero es que además no podemos ni debemos configurar un sistema de acogida y atención basado

no ayuda a la integralidad de la acogida la parcela y desde luego dificulta la lucha contra la xenofobia y el racismo en todo caso

nuestro compromiso con ser tierra de acogida sabemos que la ciudadanía lo tiene que el gobierno y entendemos que este parlamento no puede ser menos en este sentido entendemos que instar a un gobierno que ofrece compromisos a que garantice la acogida integral es lo mínimo

la acogida y el cuidado de quienes cuidan y quieran verlo o admitirlo o no han cubierto y continúan cubriendo un hueco que las instituciones no han sabido o peor no han querido cubrir la acogida y el cuidado de quienes de forma anónima o pública han decidido dar un paso adelante y ayudar en lo que desde la política y las instituciones

cubrir la acogida y el cuidado de seres humanos hayan llegado el dieciséis o el dieciocho de junio o de julio sean de mali o de marruecos necesitan nuestro apoyo y no lo están obteniendo sean o no llegadas en un momento puntual o excepcional no hay derecho ni es tolerable

porque el gobierno clasifique en función de la situación administrativa o el día de llegada

aupa zuek vecinas y vecinos de atxuri de santutxu de deusto de bilbi

y religiosas y personas en todos los rincones de euskadi que no se vinculen o sí a los colectivos que han hecho un ejercicio de voluntad popular y que hay que reconocer y poner en valor porque además es un ejercicio que nos guste o no reconocerlo le ha sacado a este gobierno los colores este verano

prevenir la xenofobia y el racismo es un elemento indispensable para poder concebir esto como una cuestión integral es nuestra aportación a esta proposición la necesidad de informar y formar a la ciudadanía para prevenir del racismo y la xenofobia

esta máxima y demostrar que cuando décimos que euskadi es tierra de tránsito y de acogida lo hacemos de verdad con los brazos abiertos y los derechos humanos en un lugar central el mismo lugar que ocupan y deben ocupar las vecinas y vecinos que aquí vivimos hayamos llegado de donde hayamos llegado porque todas somos euskadi eskerrik asko

gracias presidenta buenos días consejeras señoras y señores parlamentarios

en relación con esta iniciativa hemos llegado a un acuerdo en forma de

apoyan al gobierno y también en relación con la iniciativa que ha presentado

las dos propuestas de transacción las dos transacciones son

con la cuestión de fondo nosotros vamos a ser un poco más

optimistas o realistas en relación

y nosotros sí que pensamos que se hace todo lo que se puede hacer es posible que algún esfuerzo todavía pueda seguir manteniéndose

sí que pensamos que se hace por parte de quienes tienen que actuar lo que se puede de una manera efectiva nosotros presentamos una iniciativa en la que recogíamos el elemento fundamental para que las políticas de acogida de refugio y de asilo

los marcos de acuerdo institucional y también luego en el desarrollo de la enmienda de transacción los marcos de acuerdo social nosotros pedíamos en la enmienda de totalidad en relación con estas cuestiones de las que ya hemos hablado en este parlamento y más que hablado hemos acordado porque luego recordare la declaración institucional de hace más de un año

nosotros en la enmienda de totalidad nos centrábamos en que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que las actuaciones referentes a la acogida refugio y asilo de las personas que abandonen sus países de origen se desarrollen

el respeto a los derechos humanos la convivencia y la seguridad en europa lógicamente en ese marco de colaboración de acuerdo institucional y de coordinación pues es donde nosotros entendemos que hay que mantener este tipo de políticas es importante

con ejemplares organizaciones sociales que

la actuación en este sentido de la acogida y esa es la característica principal de la enmienda de transacción que hemos firmado la colaboración y la coordinación

en estas cuestiones las instituciones deben de desarrollar ese esfuerzo social de manera que los procesos de integración

y las políticas y los recursos normativos y organizativos también se desarrollen en ese margen de coordinación y de cooperación recordaba antes y lo vuelvo a decir la importante declaración institucional de tres de abril del dos mil diecisiete es decir eso nos unía

que estuvimos en ese acto institucional nos unía a los grupos parlamentarios nos unía a las organizaciones que se daban cita en ese marco o en ese ámbito de declaración institucional

solicitudes de cambio había propuestas había

por parte de todos nosotros había un análisis crítico de la situación

entendiendo que todo puede ser insuficiente pero que se hace lo que se puede y que desde luego hay que seguir instando a que se pueda desarrollar

el pasado martes yo no pude asistir a la reunión pero se celebró

se hablaron de cuestiones se recordaron documentos como el documento marco del gobierno para orientar de forma compartida la respuesta social política interinstitucional

interdepartamental a la crisis humanitaria es sobre las personas refugiadas en las fronteras europeas

que hay marco de actuación y hay objetivos y dentro de esos objetivos

cuestiones que son básicas y que son importantes contribuir con propuestas concretas a incrementar la capacidad de acogida

compromiso presupuestario a las situaciones y llamamiento de urgencia que con el punto de vista humanitario se presentan en cada momento apoyar y desarrollar proyectos de cooperación

euskadi tiene voz impulsar en la sociedad vasca iniciativas de armonización y divulgación orientadas a promover los derechos humanos y solidaridad con el proyecto cultural del país

marco de actuación es que los objetivos ya están efectivamente podrá haber errores o podrá haber cuestiones mejorables pero yo creo que esta sociedad camina en relación con la sensibilidad también vuelvo a decir me

gustaría que se huyese de los discursos apocalípticos y del que todo está fatal y de que no se hace nada

hay capacidad de actuación y hay actuación es decir vamos a analizarlo primero

en esas claves hemos firmado con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo socialista una enmienda de totalidad que recoge esos principios de los que hablábamos antes pero también la posibilidad de seguir trabajando es decir desde el punto número uno

de esa cooperación y de esos marcos de actuación con otros gobiernos que tienen mucho que decir pues para que la maquinaria esté bien engrasada

mucho mejor engrasada pero eso es lo que garantiza además

de una manera efectiva y lo puede hacer cada vez mejor y eso esperamos eso es nuestro deseo también hablamos de que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que trabaje de manera coordinada con el resto de instituciones y entidades tercer sector que trabajan en el ámbito de la inmigración para poder dar respuesta humanitaria de emergencia a estas personas y entendemos que las instituciones en esa colaboración social con organizaciones no gubernamentales con asociaciones ejemplares en relación con los trabajos de acogida y de asilo y de cuestiones que tienen que ver con los refugiados y con las personas migrantes

importante de cooperación proactiva en positivo es decir de desarrollo de políticas de acogida también hablamos de desarrollar los planes de actuación desde luego que tienen las instituciones la colaboración con el resto de instituciones vascas para

de personas emigrantes en marcos de actuación también ya establecidos y foros de integración y participación social de las ciudadanas y también hablábamos como recordaba

la colaboración con el resto de instituciones y agentes para continuar trabajando para que

populistas antiinmigrantes de xenofobia y de la búsqueda de consensos que eviten las mismas yo creo que son elementos fundamentales la enmienda de transacción que hemos firmado es muy similar

y las orientaciones son las mismas y apoyaremos entonces lo presentado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta buenos días señorías a todos y a todas

épicos los políticos yo creo que los principios está bien resaltarlos yo creo que muchos de ellos son compartidos lo han dicho por la sociedad vasca tanto desde el punto de vista institucional las organizaciones o los propios ciudadanos y ciudadanas que colaboran

cuando en una tribuna se explica una materia

justifican el posicionamiento del partido socialista en la enmienda de totalidad que presentamos en su día y que es prácticamente igual

elkarrekin podemos y eh bildu con una única salvedad que es el tema de la dirección la única dirección que por cierto en una reunión

tanto la dirección de derechos humanos que está con el señor fernández como la propia viceconsejera de política social explicaron

el sistema de atención insisto mejorable en todo caso pero al menos muy urgente en las medidas que se tomaron

ni siquiera casi en algunas de las personas se hicieron preguntas

muchas preguntas para detallar cuál había sido ese proceso de emergencia por lo tanto sí me gusta que se hable con responsabilidad y los discursos

hay que posicionarse pero también es cierto que hay que actuar con responsabilidad

supongo que será una experiencia la verdad como ha dicho la señora agirre

para ser vivida y para conocer experiencias yo conozco otro fenómeno migratorio

no es algo nuevo no lo ha sido en la historia de la humanidad no lo va a ser en lo nuestro tampoco en el del país vasco

agirre y agradecer a las miles y miles de personas de las cuales entre ellas puedo ser yo también descendiente trabajadoras que vinieron a euskadi

diecinueve y del desarrollismo de los años

y que han sido esenciales también para el desarrollo económico y la riqueza y la diversidad y la pluralidad de nuestro país somos lo que somos porque es verdad

se fue y ha conservado sus costumbres y somos lo que somos porque extremeños

vinieron a contribuir a la riqueza de nuestro país en estos momentos nos encontramos con una tipología diferente y con una sociedad diferente es cierto hablamos de una migración de lugares mucho más lejanos y cuyo destino no tiene por qué ser euskadi la inmensa mayoría de la corriente migratoria que recibimos viene en silencio

como hace el proceso de acogida a través de sus contactos y redes establecen y buscan el modo de salir adelante

no es el perfil migratorio no es ese perfil migratorio de todas las personas que han venido este verano una escasísima proporción

se ha explicado en varias ocasiones porque no es la primera vez que debatimos sobre este asunto en este pleno

hemos procedido en las instituciones de las que formamos parte lo que nos corresponde hacer es apoyar esos procesos migratorios de las personas aportar recursos que apoyen a las personas en su tránsito para lograr su proyecto vital la migración en tránsito lo que sí ha hecho

en nuestra tierra por uno y otro lado euskadi es tierra acogedora la historia social y sociológica lo ha ido demostrando y lo estamos

por tanto lo ocurrido este verano con la llegada de personas mayoritariamente en tránsito visibiliza como he dicho ese fenómeno que se está viviendo también en el estado a nivel mundial y visibiliza la diversidad que ya existe en nuestro país coincido que el abordaje del fenómeno migratorios es una responsabilidad de país señora guanche

comparecientes del gobierno vasco no sé si en veinte o treinta ocasiones se priorizó el plan social de inmigración

de todas las instituciones con competencia en la materia de todas las organizaciones sociales que participan

lo acaecido este verano pero también en ese proceso global de atención e integración

hablaba y que en ese sentido también apoyó en esas dos horas de comparecencia en la que pudimos informarnos de cómo habían sido las atenciones por lo tanto estoy de acuerdo en que eso es lo principal debe haber un plan vasco de inmigración y así también lo ha anunciado el lehendakari

ha apoyado en lo que las competencias que pueda tener el propio delegado del gobierno diciendo que le parece la mejor manera de afrontarlo una mesa interinstitucional con participación de las organizaciones sociales y que nosotros ya anunciamos que suscribimos antes de lo del verano

del debate de esta iniciativa por lo tanto la inmigración llega a españa ya hemos visto los datos de ayer cuarenta y uno mil personas han llegado

y la mayoría de esas personas lo hace por las vías regulares hay muy pocas personas que vienen por las vías irregulares

que la mayoría de las personas lo hacen así la inmigración en tránsito es una tipología más del fenómeno migratorio que en este caso

como un país responsable en la que respecto las personas

las instituciones vascas las organizaciones que están en esa mesa las que no están que también han colaborado y han ayudado a las personas

desde el propio julio en que se creó la mesa de coordinación en la que todos y todas sabemos porque como se dijo y se explicó durante dos horas es que me da un poco de reparo volverlo a decir aquí están todas las tres diputaciones el ayuntamiento de irún las tres capitales vascas cruz roja médicos del mundo

harresiak apurtuz y la última reunión también ya se ha incorporado

de gipuzkoa insisto ha habido

y acometer esto con una responsabilidad integral liderando el gobierno vasco ese plan que se quiere para hacer una integración que respete la ciudadanía la diversidad y la pluralidad de esa sociedad vasca y la atención a esas personas y mientras tanto

han respondido en colaboración con el gobierno español a través de ese plan que nos explicaron durante dos horas en la pasada reunión el quinto plan

el propio programa de adecuación e insistieron en la voluntad de trabajar esos planes

en colaboración con las fuerzas políticas y grupos de este parlamento que estábamos sentados en ese inter grupo reunido para explicarnos esta situación

ocasiones señora guanche puede contar con nosotros para la atención y cuidado integral respecto a la dirección única nosotros

pero también es verdad que el quinto plan que ha presentado y así lo dijo la viceconsejera apuesta por la unificación de la dirección en la próxima legislatura y eso también es verdad también se dijo en la reunión yo

de nadie porque la atención puede haber tenido defectos

una llegada de emergencia y desproporcionada puede haber habido errores

en la atención a la hora de la colaboración interinstitucional también con el gobierno de españa que incrementó los recursos para esa protección humanitaria y urgente

en el inter grupo la cantidad que puso el gobierno de españa para incrementar con respecto a los también es competencia de la diputación foral

se trató en el inter grupo y también sobre todo no escuché

a que la actuación había sido de falta de cuidado de

un bocadillo y un camastro claro que no consiste en eso y yo creo que las instituciones vascas la respuesta que han dado insisto puede ser mejorable

puede ser definida como se ha definido por algunas personas

folio por folio línea por línea cuál había sido la actuación no solo del gobierno vasco sino de las diputaciones de los ayuntamientos de las organizaciones sociales

las noticias eran preocupantes generaban alarma

sobre todo a bilbao donde no contaban con una red de apoyo y que en ocasiones se veían abocadas a dormir en la calle

tener claro que la mayoría de estas personas se encontraban en tránsito en nuestro territorio que su idea era seguir su camino hacia otros países del norte europeos

ha habido problemas de falta de información de desconocimiento respecto al número de personas que se dirigían a euskadi sobre sus circunstancias personales como pueden ser familias que podían venir con menores se desconocían esos datos hasta que llegaban

lo cual ha dificultado el establecimiento de los recursos ad hoc para estas personas de forma previa a su llegada

en que llegaban a euskadi además se dan diferentes situaciones entre las personas que llegan algunas

y aunque por supuesto que todas ellas son merecedoras de protección

procedimientos normas e instituciones involucradas no son las mismas como usted muy bien conoce señora guanche

dependen del gobierno estatal y su procedimiento está regulado en el estado de acuerdo a normas europeas e internacionales hay que recordar en este punto

ahora con el cambio de gobierno lo conseguimos a ello hay que añadir los diferentes niveles institucionales en euskadi con competencias propias gobierno vasco las diputaciones forales y los ayuntamientos

se calcula que de la gente que ha llegado este verano únicamente lo digo entrecomillado

en quedarse en euskadi lo digo lo de únicamente porque las noticias parece que es que están viniendo hordas de personas etcétera es un tres un cinco por ciento de las personas que están viniendo lo cual supondría como unas ciento sesenta personas de las

que han pasado por euskadi durante este verano es momento ahora de pensar en el medio

es imprescindible la colaboración interinstitucional y el grandísimo apoyo de las entidades y personas del tercer sector siempre dispuestas a ayudar el lehendakari decía ayer mismo en un desayuno que hace falta mucha pedagogía respecto a la migración y creo que la señora guanche y el señor barrio también han hecho mención a lo mismo que ha de ser

a vivir entre nosotros y nosotras y que hemos de procurarles y trabajar junto a ellas para que su integración sea plena evidentemente

lo que se debe y no es cuestión de caridad tampoco es una cuestión de justicia social y menos mal que en lo que han transado ha caído la palabra seguridad que era la originaria en su propuesta y si no le iba a aconsejar que no

en esa transacción que han logrado no vemos compromisos concretos

las menores palabras posibles con mayor contenido y aquí justo creo que igual porque venís del mundo de la abogacía es justo al revés se utilizan cuantas más palabras y vacías de contenido bueno romero

ya que usted menta la también la famosa reunión esa de dos horas

a las reuniones de ese tipo y usted debería saberlo mejor que nosotras no vamos a hacer discursos políticos vamos a recabar información y nos gusta hablar después de haber recabado toda la información analizar esos datos que nos ofrecieron durante esas dos horas y luego hacer nuestro discurso político llamó muchísimo la atención también que ese plan que el quinto plan de inmigración que se presentó en el mes de junio

con qué previsión se hacen estos planes que caducan en apenas tres meses y también me llamó muchísimo la atención

la propuesta de crear una dirección específica para la migración y para la interculturalidad le pregunté directamente a los tres representantes del gobierno que estaban allí y me dijeron que les parecía muy bien que era natural que antes ya había existido y que precisamente venía recogido en este plan era lo que queríamos

no termino de comprender ciertamente ya que afrontando el tema de la reunión y luego explicáis una y otra vez que era una situación de emergencia no sé

emergencia en lampedusa no sé lo que dirán la verdad bestetik arregi andrea

partes no sé si me discurso ha sido apocalíptico o ha sido épico no sé si mi euskera

y tengo la humildad de reconocer que tal vez no me he expresado correctamente pero sí que tengo la sensación de que aquí ha habido

el discurso en ningún momento se ha dicho que no se haga nada en ningún momento se ha dicho que todo esté mal hecho

yo lo repito señora romero cuál es la discrepancia respecto a estas enmiendas que hoy se presentan por un lado partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi y partido popular y por otro lado elkarrekin podemos y euskal herria bildu no solo es la diferencia respecto a la dirección de emigración sí o no es que

se lo han cargado y eso para nosotras desde luego es un punto de discrepancia insalvable podríamos hablar largo sobre cuestiones técnicas pero yo entiendo que lo que se debate en esta cámara es lo político agradeciendo los consejos sobre cómo elaborar la oratoria en esta casa sí

en mal camino respecto a la situación de los niños en ese intergrupo en el que hablamos y yo insisto

no era el momento de elaborar discursos o posicionamientos porque el inter grupo es a puerta cerrada porque íbamos escasa de tiempo

por eso hoy se manifiesta posicionamiento cuando hablamos de niños

se dijo por parte de la viceconsejera

que había una voluntad del gobierno vasco por liderar

desde luego lo que sí hay es una voluntad por parte de elkarrekin podemos de trabajar en este tema nosotras hemos presentado en verano como sabrán una denuncia ante fiscalía por el hacinamiento sistemático la situación de los niños en euskadi no es de ayer el ararteko viene denunciando

dos mil cinco y estamos en el año dos mil dieciocho

responde a no apostar por cumplir la ley de protección a la infancia sean de donde sean son niños y merecen ser tratados como dice la ley dicho esto señora arregi gracias por

el conocimiento que tengo sobre los procedimientos y desde luego creo que es obvio que a nuestro grupo parlamentario nos preocupa y nos ocupa desde antes de estar aquí

cuando nos marchemos por eso en este verano durante el momento de la crisis en aras a

respetuosas y responsables pero eso no significa que tengamos que comulgar con todo lo que hace este gobierno o que perdamos nuestro derecho a la crítica solo faltaba nosotras manifestamos de nuevo nuestro derecho a la crítica en el cómo están haciendo las cosas porque desde luego no estamos de acuerdo en todo y hay cosas en las que no estamos de acuerdo

a la crítica sobre como han hecho las negociaciones en esta proposición y la falta de voluntad de acuerdo porque sí que creemos que había mimbres para llegar a un acuerdo con compromisos

por lo menos desde nuestro grupo parlamentario no hemos sentido que se haya trabajado esa posibilidad y desde luego manifestamos

de viaje que dicen cosas como hay estudios policiales que dicen que hay un millón de inmigrantes en las costas libia que están planteándose

son sus socios hoy en este tema nosotras

la dinámica parlamentaria pero si a dejar claro que nosotras venimos a defender el derecho a la vida con mayúsculas y venimos a defender que la migración hay que entenderla como una oportunidad y no como un problema frase que está en la sexta palabra del documento

del gobierno al que me he referido antes no sirven de nada en nuestra opinión los marcos bonitos si a la hora de la verdad hay un fondo que no se corresponde besterik ez

gracias presidenta brevemente señora agirre les llamaba la atención nuestra mención en nuestra

es básica es decir cuando hay movimiento de personas cuando hay colectivos que se mueven la seguridad es básica pero para qué para la protección de esas personas y eso es también vienen en de eso hablamos todos la cuestión de seguridad interprétela

es que garantice la protección de las personas el respeto a los derechos humanos la convivencia y la seguridad en europa

a reglón seguido de que hay riesgos de populismos de racismos de manifestaciones de xenofobia razón de más aun para que la seguridad tenga un protagonismo en todas estas políticas que tienen que ver con la acogida con el asilo con el refugio

sorprendente que bueno que a usted le extrañe esta mención de algo

precisamente las políticas en las que se encaja ha hecho

una cuestión paralelismo así como fácil usted viene del periodismo

nosotros venimos del derecho y nos gusta la palabrería no ustedes muchas veces lo que buscan son efectivamente más ligado al periodismo los titulares

y lo que hay que hacer es trabajar y reconocer que se están haciendo cosas que se pueden hacer más

del año pasado y bueno y luego el trabajo dentro de los marcos de actuación y de colaboración

la cooperación la colaboración interinstitucional y social será palabrería eso de lo que hablamos pero es así es

esas declaraciones que todos nosotros hemos hecho con otras entidades y con otras asociaciones y con otros colectivos esos marcos de actuación que forman parte de la iniciativa política

que se desarrolla en toda esa cuestión y por eso yo creo que no hay palabrería le podrá a usted parecer que sí pero no la hay porque hay concreción en lo que nosotros décimos en cada uno de los cinco puntos y algunos de ellos

han propuesto y señora guanche decía que se ha caído o que no el máximo reconocimiento a las asociaciones bueno lo hemos hecho en la tribuna pero consta

décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que trabaje de manera coordinada con el resto de instituciones y entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la inmigración

y la capacidad de hacerlo y desde luego se hace y en cualquier otro documento y vuelvo a referirme

o a otra serie de documentos está ahí esa capacidad esa interlocución lo hacemos todos los días y lo reconocemos todos los días el otro día en el treinta aniversario de la coordinadora de las

nuestro país la cooperación y las organizaciones no gubernamentales eso lo hacemos y además lo décimos no sé

que lo digamos pero lo décimos porque no hay más que leerlo y además en el punto cuarto el parlamento vasco insta al gobierno vasco

es decir lo décimos dos veces además igual es que no se ha leído la

presidenta empezaré por la señora arregi con el desarrollo de la ley de extranjería efectivamente

las gestiones del delegado del gobierno ante las comisarías para poder agilizar los trámites de la primera cita

otros lo hacen en menos tiempo pero lleva tres meses y

de unos presupuestos y un sostenimiento de un gobierno en las circunstancias que están y espero que todas las fuerzas políticas colaboren

subrayarlo porque me parece necesario para afrontar el tema del asilo a ver ser inmigrante creo que no es delito es

todos en la cárcel es una obviedad yo no sé si es palabrería yo creo que no yo creo que es un posicionamiento

palabrería no es delito y yo creo que la mayoría de los grupos parlamentarios de las personas que estamos aquí lo pensamos y además no se lo echamos en cara a ningún otro grupo parlamentario yo no soy periodista qué se le va a hacer pues a lo mejor soy de los de la palabrería del derecho

es jurídica pero lo que yo he intentado plasmar en esa enmienda de totalidad que fue acogido primero

y fue el hecho que lo he dicho antes esa atención integral aquí no hablamos solo

yo no he hablado eso es excepcionalidad y por eso se presentó la iniciativa

pero nosotros no creemos que hay que afrontar la excepcionalidad señora guanche y lo sabe

hay que aceptar y acertar con el tratamiento integral de la materia

yo no voy a dar lecciones de oratoria a nadie yo no he sido la que ha dado lecciones de oratoria

pero tampoco voy a consentir que a mí me digan que cuando yo hablo de menas hablo de cosas con los niños y niñas porque no hablo de cosas

que no hablamos de cosas sino que hablamos de personas que nos importan y de las que nos hemos

en que la situación era muy difícil y usted me consta que lo conoce de nuestro esfuerzo por lo tanto no me lo voy a tomar como algo personal

el propio plan dice que será la próxima legislatura qué me gusta como grupo socialista menos pues sí pues sí señora

pero es cierto que por fin se pone en un documento que caminamos a esa única dirección

el trabajo que están haciendo donde no han llegado las instituciones o donde hemos podido fallar pero también la señora guanche decía que era otra de las diferencias en la enmienda presentada

partido nacionalista y el grupo popular eso no se cuestiona es que no permito que se cuestione porque nosotros trabajamos con ellas con ellas y con las asociaciones

procuran cuando la persona se queda definitivamente a vivir en euskadi esa integración total la estrategia del gobierno

que un gobierno ante situaciones que se producen en su país y que tienen que ver porque aunque sea extraordinario ha podido haber fallo no

hombre señora agirre es lo menos que puede hacer un gobierno

eso le molesta pues no sé si le molesta a mí me parece que si tienen ustedes señores

qué reconducir para que esto sea de verdad una atención integral lo hagan no voy a contestar a lo de los socios porque es parlamentaria los que hoy no son nuestros socios efectivamente son la mayoría de ocasiones

del gobierno es la mayoría parlamentaria es algo lógico en democracia y algo

con el partido popular hemos consensuado es una transacción que se ha quitado ese documento y que refleja lo que queríamos decir desde el partido socialista

a consentir es que nadie interprete lo que nosotros décimos lo que nosotros décimos lo décimos nosotros aunque algunas

konpontzen respecto a la señora guanche que decía que había habido falta de voluntad de acuerdo a mí cuando ayer

que habíamos acordado me llamó la parte proponente como es normal y yo

lo que teníamos acordado y le dije que estábamos abiertos a si se quería incluir alguna cosa más por lo tanto falta de voluntad por esta parte no creo que haya habido ninguna

las menciones que ha hecho de que estos son sus socios a los que ha demonizado con unas declaraciones que han hecho son los socios con los que ustedes las mismas declaraciones han hecho esos supuestos socios nuestros en esta iniciativa

siguiente que se va a debatir en el punto siguiente exactamente las mismas declaraciones han hecho los representantes de ese partido al que usted en un caso demoniza y en el otro firma con él acuerda y lo cual me parece muy bien como decía la señora romero

firmo y cuando no no creo que

a veces se han buscado titulares y fotos también en la prensa etcétera dentro de la legítima crítica pero a veces buscando esa crítica que iba detrás de las instituciones no hacen nada y nosotros tenemos que hacer buscando esa foto y ese

que creo que no se corresponde desde luego con la realidad seguimos insistiendo en que evidentemente hay fallos en que hay muchas cosas que mejorar pero lo que no puede quedar

pública es que las instituciones no se han movido que no han hecho absolutamente nada porque eso no es cierto y muchas de las veces se han ido buscando mediante fotos

intentar relacionar el que se estaba trabajando desde lo social y no se estaba haciendo nada desde las instituciones no he dicho que usted lo haya dicho he dicho que se está buscando

que flaco favor hacen algunas de estas declaraciones a lo que en realidad estamos buscando

por lo menos así lo hemos manifestado que es lo mejor para las personas que vienen a quedarse con nosotros por lo tanto creo que fuera demagogias fuera discursos racistas xenófobos por parte de todos y de nosotras y creo que debiera desde luego quedar fuera del debate no del debate sino del pim pam pum político

y aportar en positivo creo que es bueno para conseguir el fin que estamos buscando todos y todas

josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

sailburuak legebiltzarkideok euskadi tiene un problema con la calidad del aire

sobre la calidad en sí misma que también sino sobre todo por la credibilidad que tiene el trabajo institucional que se está haciendo para proteger esa calidad del aire y lo voy a ilustrar con una carta al director publicada el pasado dos de septiembre en un

qué pasa en durango esa fue la pregunta de un oncólogo de un hospital de bilbao a un durangués con un carcinoma pulmonar yo respondí por él con otra cuestión es durango el pueblo más contaminado de españa como algunos afirman no lo sé

el que más riesgo corre hay una empresa que más o menos todos conocemos que momentos antes del cambio nocturno desprende unos gases muy tóxicos que hacen el ambiente irrespirable

están jugando con la salud de todo un pueblo si las autoridades locales no toman medidas drásticas sobre el asunto será el pueblo el que algún día alce la voz

he luchado fuerte para superarlo porque quiero seguir denunciando públicamente todo lo denunciable muy pronto cumpliré los noventa y uno años y deseo fervientemente que los que vienen detrás alcancen mi edad

en esta carta se desprenden dos cuestiones fundamentales una que hay una percepción de riesgo

dice el autor que durango es el pueblo que más riesgo corre y dos hay una sensación de abandono y de desinformación cuando dice que las autoridades locales no toman medidas drásticas sobre el asunto y que será el pueblo si no el que algún día

percepción de riesgo y sensación de abandono y desinformación llevan a una pérdida

en las instituciones que deberían estar protegiendo y promoviendo una mejor calidad del aire en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y no solamente sucede en durango hemos tenido noticias de manifestaciones en güeñes en bilbao en barakaldo en getxo en erandio en elorrio hay muchos municipios que están preocupados por la calidad de su aire

en durango por lo que me dicen después de una encuesta realizada por el ayuntamiento la preocupación número uno de la ciudadanía no es el autogobierno no es el derecho a decidir ni siquiera es el empleo la preocupación número uno de la ciudadanía de durango es

la calidad del aire y por lo tanto es imprescindible que nuestras instituciones den respuesta a esta preocupación

la respuesta de un gobierno diligente de unas instituciones diligentes nunca sería la de mirar para otro lado incluso aunque se están haciendo bien las cosas aunque se estuvieran haciendo bien las cosas que no es el caso

una preocupación pero es que la realidad es que tampoco el gobierno está haciendo bien las cosas la relación entre los departamentos de salud y de medio ambiente es

cuanto menos llamativa por no decir inexistente en el plan de salud dos mil trece dos mil veinte dice el departamento de salud y lo escribe

cuando nuestro grupo le pregunta al departamento de medio ambiente dice no existe un protocolo escrito de transmisión de los datos ni a los ayuntamientos ni con el departamento de sanidad si quieren mirar que miren en la web no viene a decir el gobierno no existe una

y esto no es un problema medioambiental tengo que decirlo una y otra vez no es un problema medioambiental es un problema de salud pública y por eso nuestro grupo interpeló

de salud sobre este tema y no lo hizo al consejero de medio ambiente porque ya sabemos porque tenemos claro a día de hoy que la mala calidad del aire agrava la mortalidad lo ha dicho la organización mundial de la salud y es así el propio ayuntamiento de bilbao dice y escribe que cada año cien bilbaínos y bilbaínas fallecen como consecuencia de la contaminación

ciento catorce por enfermedades respiratorias y veinticinco por bronquitis agudas lo está diciendo la propia institución se muere la gente por mala calidad del aire se muere la gente por mala calidad del aire por lo tanto hay una responsabilidad compartida

entre el departamento de medio ambiente y el departamento de salud porque todo ello es el gobierno vasco eta erantzukizuna banatuta baldin badago

hay dos principios fundamentales a los que tenemos que prestar atención por un lado tenemos que garantizar el departamento de salud tiene que garantizar

pero por otra parte el departamento de medio ambiente tiene que asegurar que la información que pone a disposición de la ciudadanía es veraz y completa y eso

y el adoptar medidas y eso es lo que estamos proponiendo en la moción que hoy presentábamos desde elkarrekin podemos y que por suerte hemos conseguido transaccionar

hay que adoptar medidas hay que poner en marcha protocolos de coordinación que no existen y hay que poner en marcha los planes de mejora de la calidad del aire que es una obligación

tenemos que revisar esta red de control de la calidad del aire que no está funcionando correctamente y que no está dando no está dando la información veraz que necesitaría la ciudadanía

este es el panel uno de los paneles de calidad del aire que tiene el ayuntamiento de bilbao en la entrada en una de las entradas de la ciudad

calidad del aire mejorable cuando dice mejorable quiere decir que estamos superando los límites legales no es que seguimos trabajando

estamos superando los límites legales pero pone mejorable en verde

podría decir nos estamos muriendo y lo pone en verde lo pone en verde para que tengamos claro que todo va bien que todo sigue bien

no se está dando información veraz no se está dando información honesta a la ciudadanía y justo este panel está al lado del punto que ha registrado los perores índices de calidad de todo euskadi durante el dos mil diecisiete

haciendo una pequeña reflexión yo no sé porque los grupos que apoyan al gobierno no han presentado enmienda tengo dos hipótesis que por supuesto imagino que nos responderán ahora esos grupos la primera es que el gobierno no tiene alternativas y esa es la que más me tranquiliza es la que más me tranquiliza porque nosotros los demás grupos

otra cosa es que las quieran asumir o no la segunda sí me preocuparía más porque la segunda es que sigan diciendo que no existe un problema que no existe un problema si dijeran que no existe un problema es que seguirían

y este es un buen momento para recordar que sí hay un problema y que hay que resolverlo y también es un momento buen momento porque dentro de tres semanas se van a cumplir cuarenta años de los sucesos de erandio

fueron el asesinato el asesinato de dos vecinos de erandio por parte de la policía cuando participaban en las protestas

del aire que había en erandio en el año mil novecientos sesenta y nueve dos personas que por cierto todavía no han sido reconocidas como víctimas de los abusos policiales

la crónica que hizo hace varios años un periódico de tirada nacional recordando lo que había sucedido hace cuarenta años y decía para que

el municipio erandio que por aquel entonces era un barrio de bilbao llevaba años soportando las emisiones contaminantes

buena parte de la población sufría problemas respiratorios y en erandio ya habían aflorado síntomas de malestar y hartazgo entre los trabajadores y sus familias de hecho no era la primera vez que las mujeres muy preocupadas por la salud de sus hijos acudían a la plaza del pueblo a protestar de forma pacífica

molestos e insalubres en erandio cámbiese erandio por cualquier otra ciudad vasca

esta repetición produjo la irritación de un sector del vecindario que formando grupos salió a la calle a manifestarse en señal de protesta

interrumpiendo la circulación durante una hora entonces se produjo una nueva intervención de la fuerza pública para serenan los ánimos y ya sabemos cómo serenaban los ánimos en aquella época

a tiros que mataron a dos vecinos se cumplen cuarenta años de esto como digo la alcaldesa franquista de la época de bilbao

dijo hizo unas declaraciones que recogió el abc y que voy a leer también textualmente para terminar la alcaldesa de bilbao doña pilar careaga recibirá en su despacho oficial a una comisión de vecinos de erandio

así como sobre los estudios efectuados sobre la contaminación

seguiremos trabajando quería decir quiero demostrar decía

seguimos trabajando pero el problema de los gases nocivos requiere bastante tiempo y yo me pregunto tanto como cuarenta años

eta testuala da que los datos de la calidad del aire en euskadi son buenos o muy buenos que también hay datos buenos y muy buenos

simplemente estamos trasladando la realidad de los datos derivados de nuestras estaciones de medición bale pixka bat nik uste dut hori dela gobernuaren

txostena hau da contaminación atmosférica nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección hori da

cada año causa alrededor de quinientos mil muertes prematuras en europa que para el caso del estado español se convierte en unas treinta mil y para el caso

podemos estar hablando de varios miles cuando menos de muertes prematuras si estuviéramos hablando de estas mismas cifras en accidentes de tráfico son diez veces menos o en accidentes laborales habría que ver la escandalera que tendríamos sin embargo como son por contaminación de aire

es un asunto gravísimo que provoca más de mil muertes prematuras de media al día y también nos dice que el noventa y seis por ciento de los ciudadanos de la unión residentes en zonas urbanas el noventa y seis por ciento

son perjudiciales para la salud nos dice que las partículas finas las partículas finas de dos coma cinco micras provocan solo ellas cuatrocientos mil muertes al año y advierte la agencia

afecta a las personas a diario y que a pesar de que los picos de contaminación son su efecto más visible la exposición a largo plazo en unas pequeñas dosis plantea una mayor amenaza para la

no se mide lo suficiente no se mide bien la información sobre el aire no es más clara y va dando advertencias cosas que coinciden bastante con las carencias que nosotros detectamos

nos dicen que los índices de calidad del aire son herramientas que pueden proporcionar información comprensiva a los ciudadanos

los índices de la calidad del aire lo que da lugar a evaluaciones diferentes para la misma calidad

exige que los estados miembros informen a los ciudadanos sobre los posibles efectos de la contaminación atmosférica

eta konklusioetara iristen denean esaten du aunque la calidad del aire se ha visto beneficiada por la reducción de emisiones la salud de los ciudadanos sigue muy afectada

varias normas de la calidad del aire de la unión europea son menos estrictas

sobre los efectos de la contaminación atmosférica de la salud y el tribunal constató que no había garantías suficientes de que los estados miembros estuviesen midiendo en los lugares adecuados y decía que la normativa

que son mucho menos estrictas que las directrices de la organización mundial de la salud

sí buenos días gracias señora presidenta señorías señor consejero señora consejera desde el partido popular desde el grupo popular y supongo que también los grupos que apoyan al gobierno aunque

no han puesto de manifiesto su criterio a través de alguna iniciativa alguna enmienda consideramos la mejora de la calidad del aire y la adaptación al cambio climático como una de las principales

nos consta que el departamento está trabajando en leyes de cambio climático y por lo tanto entendemos que este tema les preocupa y que pasar

sobre esta cuestión en este momento se puede interpretar de distintas maneras esperemos a ver

la administración pública debe garantizar la protección de la salud de las personas y preservar los recursos naturales mediante un uso prudente y racional

define la contaminación como la presencia en la atmósfera de materiales sustancias o formas de energía que impliquen molestias o daño para la seguridad o salud de las personas el medio ambiente y bienes de cualquier naturaleza contaminantes atmosféricos que define la ley generados por actividades de producción y transformación de energía relacionados con la combustión y los generados por el transporte tenemos el monóxido de carbono los dióxidos de azufre los óxidos de nitrógeno y las particular primarias

la calidad del aire ha mejorado en los últimos cincuenta años gracias a los avances científicos

de la sociedad y de la población y a la aplicación de toda una serie de disposiciones legales pero esto todos sabemos que no es suficiente

y los datos de la unión europea se ha avanzado y mejorado pero se han reducido de manera significativa algunas concentraciones de

y del benceno las concentraciones de plomo

a pesar de estos logros pero que aún no conseguimos la calidad del aire que prevé la normativa europea y que desean los ciudadanos estamos muy alejados de los objetivos que nos hemos marcado hoy en día

son los dos principales contaminantes que comportan riesgos para la salud y para el medio ambiente además

en los últimos años se han puesto en marcha un amplio número de instrumentos legales tanto a nivel europeo como nacional y regional

por así decirlo ha habido unas modificaciones de anteriores que es la relativa a la calidad del aire del medio ambiente y de una atmósfera más limpia en europa que fija y define y establece los objetivos para europa y los criterios comunes de evaluación para

que dice cómo obtener los datos de la calidad del aire y poner a disposición de los ciudadanos esta información aquí hace mucho hincapié la unión europea

mantener la calidad del aire y de fomentar la colaboración entre los estados pero tenemos la última directiva la dos mil dieciséis la relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados

que obliga a los estados miembros a conseguir que sus emisiones anuales de dióxido de azufre dióxidos de nitrógeno compuestos orgánicos volátiles no metálicos y

dos mil veinte unos niveles o techos determinados y que en el dos mil treinta y siguientes

reduciéndose con respecto al dos mil cinco por eso la ley del dos mil siete establece que las comunidades autónomas

de la calidad del aire para alcanzar los objetivos exigidos y evitar impactos negativos

de la misma manera que dice que tendrán que hacerse planes de acción a corto plazo con medidas inmediatas para zonas o supuestos

que exista riesgo no que haya habido ya contaminación que exista riesgo de superación de los objetivos de calidad del aire y posible y que tenemos en el país vasco qué hemos hecho en estos años y

plan de calidad del aire en la comarca del alto deba en el duranguesado en el dos mil siete

en pasaia en tolosaldea en betoño en vitoria

no hay más datos no sabemos cuál es el resultado se han hecho otros planes en el urola medio y mire aquí se trabaja con cierto rigor el urola medio todos los años tiene un informe de su plan tenemos datos sabemos lo que pasa

se ponen en común los datos y la ciudadanía tiene información el que quiere tenerla señorías la verdad es que creo que tenemos mucho trabajo por hacer yo no digo que no se esté haciendo nada pero desde luego no estamos cumpliendo la ley

nos exige unos parámetros que hoy por hoy no los estamos cumpliendo y dirá usted como me decía en su día la señora tapia

los tienen que cumplir y como dice la ley del dos mil siete con el trabajo de las comunidades autónomas eso

importantísimo un campo para desarrollar planes y mejorar

pero hay cierta pasividad porque me sorprende que ustedes estén trabajando en leyes de cambio climático que parece que

y no les preocupe la calidad del aire mire hay dos cosas que el ciudadano valora dos cosas muy importantes alimentos sanos y saludables y un entorno

y el aire es el entorno del ciudadano de las personas y del medio natural y por lo tanto la responsabilidad y la exigencia y los datos que tenemos que dar al ciudadano tienen que ser los máximos y en eso tenemos que trabajar y aquí no puede haber autocomplacencia

para poner a disposición del ciudadano el mejor ambiente posible porque de ahí va a depender su salud y su calidad de vida y nos estamos jugando mucho en esto

faltan muchos datos y por lo tanto es difícil de evaluar algunas cosas y desde salud

claro que sí lo dicen los profesionales pero datos alarmantes

entiendo que nosotros desde luego lo que hemos hecho desde nuestra enmienda a la moción inicial hemos hecho un punto que dice que necesitamos

emisiones y de sus fuentes y cuál es la realidad del país vasco y también que se hagan planes de acción con medidas concretas y en aquellas zonas donde requiera especial trato pues especial trato y seguimiento de los planes estamos en hace diez años hace once y no nos hemos movido

bilbao con una densidad importante y con datos alarmantes en algunos puntos

del año dos mil quince y la evaluación que yo he visto o un pequeño informe es bastante crítico bastante crítico por lo tanto señores creo que tenemos mucho campo para actuar y en ello nos debemos implicar todos pero

gracias presidenta y buenos días a todos efectivamente

los partidos que formamos parte del gobierno hayamos presentado enmienda pues empezaré diciendo que no me lo creo porque es que este debate ustedes lo han llevado no en un municipio ni en dos ni en tres ni en cuatro ni en cinco en bizkaia

hemos hecho exactamente lo mismo en cada uno de los municipios y por qué no hemos presentado enmienda primero porque no entendemos que el mismo texto el mismo

para durango para muskiz para güeñes para legazpi da igual el pueblo da igual la casuística da igual que haya empresas que no haya empresas que haya habido denuncias que no las haya habido

y lo único que están consiguiendo es crear una alarma social en la ciudadanía que desde luego a nosotros nos preocupa y no vamos a ser corresponsables de ello y decía la señora lópez de ocariz y decía bien que todos los partidos políticos que estamos aquí

compartimos la preocupación que tienen que tener los poderes públicos asunto y efectivamente nosotros también lo compartimos pero entendemos que hay que realizar algunas matizaciones importantes en la justificación que podemos presenta en su iniciativa

al resto de provincias después de escuchar a la señora lópez de ocariz que esto sucede en todos los sitios de euskadi

entendemos que hay que matizar como digo algunas cosas siendo conscientes de que la contaminación del aire es uno de los principales motivos de preocupación no solo para ustedes para todos no solo en relación con el cambio climático sino con la afección a la salud de la población mundial la política medioambiental vasca se enfoca en minimizar esa contaminación medioambiental motivada principalmente por el transporte

haciendo que la información sobre contaminación atmosférica sea más accesible

sino también más comprensible y desarrollando la capacidad de anticipación y de actuación

por cierto que no lo dice el gobierno vasco que ha sido reconocido incluso por naciones unidas

pero solo cuando les conviene en ese sentido se menciona en la justificación de la moción

entre otros en unos casos relacionados con episodios contaminantes provenientes de focos conocidos y en otros derivados de la existencia de fuertes olores de naturaleza química de origen desconocido pero como les digo a ustedes les da igual de dónde vengan a dónde van si actúa el gobierno o no

y en todos los incidentes que se han puesto en conocimiento de las autoridades responsables de la contaminación atmosférica se ha actuado con todos los medios a disposición del gobierno

como con la utilización de estaciones móviles se ha trabajado en la identificación del foco origen de la contaminación se ha actuado tanto desde el punto de vista de la contaminación atmosférica

cuando han sido consecuencia de una mala praxis por parte de las empresas

de proposiciones no de ley y en este caso a través de una moción se afirma que la respuesta del departamento de medioambiente política territorial y vivienda

y o de la gestión de la red de calidad del aire vasco manifestación que desde luego no podemos compartir todas las explicaciones que conocemos sobre las diferentes situaciones que se han vivido en los últimos años

lo que pone de manifiesto es la diligencia en la actuación tanto de los responsables políticos de los responsables técnicos en lo que tiene que ver con la calidad del aire

lo que pone de relieve es el celo de la verificación de la información en la red

se obtienen de forma continua veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año en las estaciones de control fijas son transmitidas a la unidad central de manera automática

fijados para cada detector en cada estación son publicados y puestos a disposición de la ciudadanía a través de la página web de forma automática y prácticamente

un instrumento fijo no quieren fijo cuando es móvil es que pertenece a la empresa cuando no pertenece a la empresa es que es del gobierno como en el caso de petronor

desconfían absolutamente de las empresas y en el entretanto van generando una preocupación a la ciudadanía sin alternativas señor becerra porque el gobierno tiene alternativas ustedes sueltan lo que a ustedes les parece

nada de lo que el gobierno está realizando pero

no llega a cinco minutos la moción que ustedes presentaban señores de podemos tenía era

que voy a intentar explicar el por qué no vamos a apoyar esta iniciativa para que

el primer punto hablaba de velar por garantizar la calidad y hacer accesible de forma sencilla la información a la ciudadanía la calidad del aire y en concreto la medición de la misma es una actividad regulada legalmente pero a ustedes no les parece suficiente la ley el acceso a todos los datos de todas las estaciones fijas de la red vasca

en la web del departamento de medio ambiente para su acceso por cualquier persona pero no ahora sucede desde hace muchos años y el señor becerra estoy segura que lo conoce

acceso el punto dos hablaba de la actualización de los parámetros de la red de calidad del aire con los criterios de la oms

con los criterios de protección para la salud que marca la oms hay que destacar que las directrices que marca sobre la calidad del aire publicadas en dos mil cinco

clave que entrañan riesgos sanitarios y que están actualmente en revisión

tiene fecha de publicación para el año dos mil veinte la oms esa a la que ustedes también se refieren los índices de la oms son índices de referencias globales que establecen un objetivo final a alcanzar

para ir gradualmente mejorando la calidad del aire que son esos índices a los que se sujetan los gobiernos

como los gobiernos autonómicos para ir adaptándose a lo que en los futuros

si bien el perfil del aire que publica el departamento incluye una mención a los valores de la oms de forma totalmente voluntaria que no es obligatorio para mejorar el conocimiento del ciudadano

la distribución de las cabinas de medición de calidad del aire se realiza atendiendo a criterios legalmente establecidos no a lo que el gobierno quiere tapar o no tapar sino a lo que establece la ley ahí está la directiva dos mil ocho barra cincuenta que es una de las que obliga

más altas de contaminantes y nadie representativas de la exposición de población y donde los niveles parece que pueden preocupar o que parecen que a veces

anualmente desde la red de control de aire de euskadi se evalúan los niveles de contaminantes

para conocer los niveles de contaminación en aquellas áreas donde no existen cabinas de medición y luego a largo plazo se van realizando estudios estadísticos para ver

el punto cuatro hablaba del departamento de salud de informes preceptivos en lo que tiene que ver con la calidad del aire entendemos que

tasados y regulados legalmente y no entendemos que el departamento de salud ni mucho menos los ayuntamientos

al respecto el punto cinco habla de hacer públicos en tiempo real los resultados esto ya se realiza veinticuatro horas

en web y en aplicación móvil el punto seis habla de protocolo de actuación entre sanidad

lejos de colaborar y tener relaciones parece que cada uno actúa como departamentos estanco porque no es verdad hay una colaboración estrecha entre los dos departamentos y mucho más cuando en municipios concretos surge

esto ya se está haciendo hablan en el ocho de la mesa de trabajo la coordinación con salud como les digo es permanente y como digo mucho más cuando existe un incidente en conclusión

le preocupa la contaminación atmosférica y las consecuencias veo que como ustedes preocupación compartida pero nos preocupa también y no menos

esto es la política del calamar sueltan y luego ya veremos lo que sucede y

no porque no nos preocupe la contaminación del aire sino porque el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer porque se está cumpliendo la ley y porque ustedes están utilizando este tema para hacer política

si suman lo sacan y aquí sabían lo que iba a pasar y si no parece mentira que no conozcan a este portavoz

porque no se puede hacer una iniciativa con el mismo texto da igual para qué porque se está cumpliendo la ley porque hay transparencia y acceso a la información

cuando alguien quiere llegar a un acuerdo lo menos que tiene que hacer es intentar contar con las otras partes y en aras a la verdad diré que el señor otero se puso en contacto con nosotros pero hombre la persona que

tener intención de acordar las dos partes porque ustedes saben que con la moción

atmosférica es el principal factor ambiental asociado a muerte prematura y a enfermedades evitables tal y como se ha dicho

con un diagnostico realista de lo que ocurre y es que los parámetros de contaminación que se asocian a la salud

por debajo en la gran mayoría de los casos de lo que marca la

en el informe que hace el gobierno vasco a cerca de la calidad del aire lo dijo también el señor arriola en grada a grandes rasgos es buena y comparativamente mucho mejor no solamente con el resto

con europa y lo que me resulta chocante es que los dos

digamos el proponente podemos y también usted señor otero

al principal problema en cuanto a contaminación que es el coche es el automóvil es el transporte y me parece muy llamativo que llevamos cuarenta minutos de debate

lópez de ocariz ha hecho alguna mención pero hasta que ha llegado la

ninguna mención al ochenta por ciento del problema que es el coche yo no sé si es más fácil interpelar sí usted sí lo ha hecho ya lo ha dicho no sé si es más fácil interpelar

pero lo cierto es que me llama la atención que no se le ponga nombre y apellidos este es un problema cuantitativamente urbano y cualitativamente urbano también

la medición digamos menos favorable se ha dado

podemos concretar dado que la mayor urbe que tenemos es bilbao y podemos ir

se ha reducido a treinta kilómetros por hora la velocidad máxima ekologistak martxan en su último informe que también analiza la calidad del aire del dos mil diecisiete indica que o propone

es una ciudad con una red de transporte público muy eficiente

el precio razonable la eficiencia la frecuencia del servicio es reseñable es una ciudad densa que invita a caminar y es una ciudad que bonifica en sus ordenanzas fiscales la compra del vehículo eléctrico

por tanto bilbao cumple con todas las recomendaciones

los ecologistas y haciendo un ejercicio de realismo y de responsabilidad y yendo al fondo

queda aún muchísimo margen en las autoridades competentes para atajar el problema

y gobierno vasco el margen de maniobra cada vez se estrecha más se están llevando a cabo

la compra del diesel en alemania para renovar la flota de vehículos pero bueno es una transición que todos entendemos que será bueno eso

gaudela paso a continuación a analizar el texto

es un mix de lo que proponían pp elkarrekin podemos y bildu hablan

ofrecer una información más accesible visual a los ciudadanos y yo y podemos hacer un ejercicio práctico ahora mismo uno pone en google aire euskadi clickea sobre euskadieus y solamente con dos clicks accede

becerra índice de calidad del aire buena de una forma visual y sí con colorines pero es que además vienen diez parámetros medidos con la cantidad

no tan lejos de los veinticinco de la oms pero por debajo partículas móviles de diez micras

diez parámetros de una forma visual y además da la opción

proporciona la opción de conseguir gráficas graficas que son

en segundo lugar se solicita un protocolo de actuación conjunta entre los distintos departamentos que tiene que ver con el asunto el del señor arriola

y el de salud y yo según tengo entendido y lo tengo entendido de primera mano ya existe

muy importante e incluso se está trabajando en darle

en conjunto y por tanto eso ya se está haciendo y en tercer lugar ustedes proponen un mayor debate o una mayor participación a la hora de juzgar si la red que hay actualmente la fija y la móvil está bien ideada y

jarriko nuke rojo andreak ondo azaldu du apur bat dela alarma sortzea y yo señor becerra en este punto le quiero

de anécdotas de dudosa fuente el médico el vecino con una falta

en su discurso si estamos hablando de un problema de percepción de la contaminación de la ciudadanía lo menos

y no venir con casos que no sabemos muy bien de quien son

ya lo ha adelantado la señora rojo vamos a votar en contra de su iniciativa eskerrik asko eskerrik asko

arruabarrena me llama la atención que en su intervención haya dedicado un esfuerzo

entre firmantes malos y firmantes buenos de esta iniciativa y también me llama la atención que haya querido resaltar que el origen del problema es el tráfico y que nosotros no hayamos dicho nada no hemos dicho ni que sea el tráfico ni que sean las empresas no hemos dicho

la calidad del aire tiene múltiples orígenes y además dentro de nuestro texto transaccional y como aportación de la señora lópez de ocariz ya hemos incluido analizar

ha centrado el asunto posiblemente de una forma más elegante que yo diciendo que ni conseguimos que la calidad del aire sea la que desea la ciudadanía

pueblos y ciudades ni estamos poniendo a disposición de la ciudadanía la información adecuada eta otero jaunak gehitu du gehitu du horretaz aparte

dentro de todas sus intervenciones no puedo negar que la de la señora rojo

no está promoviendo una alarma social hoy en la tribuna hay gente que viene de durango y han venido

cuando este grupo todavía no se había referido a la contaminación en durango ya el señor otero preguntaba por ella porque fue

pero todavía antes en durango antes de la moción que se ha defendido esta semana pasada en durango se habían presentado cuatro mil firmas

apoyando una investigación de la calidad del aire en ese municipio por lo tanto la alarma social está en la calle lo que nos hemos limitado algunos grupos es literalmente a traer esa preocupación aquí a traerla aquí y lo mismo en güeñes

todos los grupos políticos incluso el suyo señora rojo incluso el suyo

es porque elkarrekin podemos va a sacarles de su casa no y está pasando esto en muchos muchos municipios y ante esto pues ustedes dicen el gobierno tiene alternativas pues

pónganse de acuerdo porque yo sospecho que lo que sucede es que ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo sí se ponen de acuerdo para tumbar una ilp y otras cosas pero no para lanzar alternativas

a la aplicación de móvil que permite ver los datos de forma instantánea

que será bueno no lo va a ver tan grande pero ya se lo voy a poner yo lo que se encuentra todos los días y en todas las estaciones

y se acerca al máximo legal permitido desaparece la señal señor arruabarrena desaparece la señal y sabe lo que sucede

es más lista de lo que parece porque la gente es más lista de lo que parece y trastea un poco por internet

aplicaciones estadounidenses chinas y hasta de canarias

sí los da y donde el gobierno deja un agujero la aplicación de internacional te pone en rojo que está superando los límites

y entonces dígame usted señor arruabarrena dígame usted señora rojo quién está alimentando hoy en día la alarma social no dando la información que tiene que dar puntual y contrastada y evidentemente nuestro grupo

y teníamos todas las enmiendas a las mociones antes de que se registraran

a las negociaciones ni a las conversaciones internas le felicité a la señora rojo le pregunté qué tal las vacaciones y le dije vais a enmendar nuestra moción

porque todo lo de medio ambiente se consensua me dijo se llega a acuerdos y aquí estamos y no hubiera dicho esto si usted señora rojo no hubiera dicho que evidentemente no es voluntad de nuestro grupo llegar a acuerdos por supuesto que es llega a acuerdos de hecho

señora rojo el movimiento andando la voluntad de acuerdo se hace a través de una enmienda ustedes no hacen enmiendas después qué voluntad

y el texto no es el mismo que se está presentando en los ayuntamientos y usted ha hablado aquí de informes preceptivos de ayuntamientos que no existe la transaccional vuélvalo a mirar por favor pues se ha equivocado

yo le remito al informe del tribunal europeo de cuentas con el que he empezado

sigue muy afectada por la contaminación atmosférica y también pasa aquí por favor vaya al tribunal europeo de cuentas a decirle que está haciendo alarmismo

información accesible y comprensible pues bien por qué nos empeñamos en decir que a nivel general es buena si el tribunal europeo de cuentas nos dice que la mayor mortandad por contaminación

viene por las partículas dos coma cinco y resulta que tenemos que según los valores objetivos según usted de la oms tenemos

que están respirando de media anual valores que son nocivos para la salud según la oms es que no cuadra lo que está diciendo o sea si son los valores objetivos y tenemos estos valores reales

y por cierto para hacer el desagregado y para hacer la comparativa

no me he podido ir al informe anual de la evaluación de la calidad del aire que publica el gobierno vasco me he tenido que ir al informe

porque es quien lo hace porque el gobierno vasco no lo hace hace una leve referencia

con respecto a las directrices de la oms vale eta gero nik uste dut

usted ha dicho que en dos clics yo compruebo que la calidad del aire

es buena y yo también lo he hecho pero es buena según esos índices que están vamos a decirlo así

nos está avisando el tribunal de cuentas europeo

y es curioso porque si nos vamos a la agencia europea de medio ambiente

y que me parece que es muy interesante y a ver si se ve en la pantalla que esos datos que dice usted a tiempo real que son datos buenos en durango

se fijará que las partículas de diez micras están en un nivel de cincuenta y siete ahora mismo

en el rango de mala calidad del aire baina

zurea da hitza sí brevemente por aclarar algunas cuestiones bueno los niveles de contaminación vienen generados por el coche vienen generados

generados por la arquitectura vienen generados por la agricultura por el medio natural

es un dato que ha salido estos últimos días es que hay un porcentaje de coches que generan el ochenta por ciento de las emisiones de los vehículos que eso es distinto los coches antiguos pero creo que el porcentaje en global no llega a ese dato

es muy importante hacerlos que tenemos que cumplir la ley del dos mil siete que nos dice que las comunidades autónomas tenemos que hacerlos planes y programas de mejora

han tenido esos planes qué se ha hecho dónde nos hemos quedado algunos sí pero funciona uno con cierto rigor por lo tanto es muy importante mire

hace seis meses que se ha aprobado el plan dos mil diecisiete dos mil diecinueve que cambia algunos parámetros que había antes que se ha adaptado a la

nuevos parámetros que nos dice que tenemos que evaluar especialmente

los óxidos de nitrógeno que son especialmente con especial atención

el amoniaco los compuestos orgánicos volátiles no metánicos en fin creo que tenemos un trabajo importante y que esos datos hay que

porque lo que genera alarma es el ocultismo eso genera alarma

estaba y estoy si voy mejorando o no y la administración tiene que hacer un esfuerzo importante porque es la responsable de medir estos datos y de trasladarlos a la ciudadanía y de hacerlos con rigor y sobre todo en aquellas zonas de especial concentración de algunas actividades

esto pero en algunas zonas del país vasco con una densidad importante de algunas actividades que pueden ser que tiene emisiones pues hay que hacerlo y yo tengo que generar a la ciudadanía del entorno

pero no comunicar eso sí que genera alarma porque entra la duda y la desconfianza por lo tanto señorías

de manera intensa adaptarnos a la normativa y cumplir con los parámetros que nos dice la directiva europea y el plan también el último plan que se ha aprobado en dos mil siete sobre la calidad del aire

creo que debiéramos todos ponerla en práctica que es la cortesía parlamentaria sumado a contar la verdad

y educadamente aguanto entonces le voy a decir una cosa primero no se cuentan las conversaciones privadas en una tribuna señora presidenta por favor

que usted y yo mantenemos o que mantenemos con cualquiera sabe por qué porque entonces igual empezamos a tener menos porque dejaré de fiarme esta es una cuestión de confianza

usted me preguntó qué tal el verano que por cierto fantástico y luego usted me dijo que si íbamos a hablar del tema de la contaminación atmosférica porque usted consideraba que era un tema importante que acordar y yo le dije hombre claro que hablaremos siempre hablamos del tema del medio ambiente

creo que va un trozo entonces por tanto primero no se cuenta lo privado

y esto es una cortesía parlamentaria que creo que todos nos debiéramos de aplicar porque conversaciones en los despachos tenemos todos señor becerra todos entre todos no le digo más segundo usted dice quién está alimentando la alarma social pues sinceramente ustedes

porque yo entiendo que el ciudadano acuda a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios en este caso para plantearnos su preocupación y más a los partidos que tienen representación en los ayuntamientos pero cuando a alguien le vienen con una preocupación

porque este grupo que yo represento pone alternativas sobre la mesa

y entonces yo les digo primero ustedes no dan credibilidad a los datos que aporta el gobierno ustedes deslegitiman

de las que el gobierno se ha dotado como son las cabinas unas móviles y otras fijas

no son suficientes es imposible llegar a un acuerdo si ustedes creen que el gobierno miente que mal utiliza los instrumentos y que las leyes son cuando menos permisivas es muy complicado llegar a un acuerdo con ustedes porque usted niega la mayor y es muy complicado ser capaces de sentarnos entonces dos no discuten si uno no quiere

y ustedes en este tema no han querido acordar y usted señor otero me hablaba de que no es el mismo texto y le vuelvo a repetir

me refería a la moción original que es con la que yo me preparo las intervenciones

y la enmienda original era textual en cada uno de los municipios de bizkaia

con la realidad industrial de durango y no se puede utilizar el mismo texto

porque todo no es igual y entonces los datos están

que la gente es muy lista que yo nunca lo había dudado creo que a veces infravaloramos a la gente y que entonces

se para no sé en qué momento dice usted que no es verdad pues que hay otras aplicaciones

que oye dan otros datos diferentes y yo le puedo preguntar a usted por qué tiene más credibilidad la aplicación estadounidense que la de mi gobierno

hombre por favor eso es demagogia y eso es decirle a cada uno lo que quiere escuchar y usted forma parte de un parlamento que lo dirige un gobierno que tiene unos instrumentos si no le gustan trabaje por cambiarlos

y termino como he empezado si esto va a empezar viniendo con contar cosas que no son verdad

que en este parlamento medio ambiente normalmente los temas salen acordados pero lo que no puede ser es que ustedes repliquen este debate en todos los ayuntamientos ustedes sabrán por qué dando eco donde les interese y donde consideren que lo van a ganar

oiga y que el pnv y el pse voten lo contrario que los demás pueblos

son los mismos en otro momento nos hubieran tachado de incoherentes dicen lo que quieren donde les interesa los oligopolios de las empresas

concluyo diciendo que este debate era un debate de sordos ustedes sabían desde el principio lo que íbamos a decir los dos partidos que formamos parte del gobierno la ley en la mano

creando frustraciones que es lo que hacen ustedes y luego

y creo que nosotros debemos atenernos a los umbrales que marcan las normativas cumplimos la normativa europea cumplimos los parámetros de la oms y bueno ahora parece que hoy solo hay que fijarse en el tribunal europeo de cuentas ese que nos lo ha repetido cuarenta veces

hoy da igual lo que diga la oms hoy da igual los reconocimientos de naciones unidas porque a usted no le interesa
pues mire si hay incumplimiento de la ley ya sabe usted donde tiene que ir eskerrik asko rojo anderea

usted en su moción menciona durango elorrio muskiz güeñes zorrotza y san ignacio

he estudiado en durango he trabajado siete años en zorroza y ahora vivo cerquita de san ignacio con lo cual mire y no tengo un tercer ojo quiero decir

afectado por la contaminación como los ciudadanos que nos están escuchando con todo el respeto hacia ellos por supuesto uno de ellos por cierto responsable político

en segundo lugar aquí no hay firmantes buenos ni firmantes males pero hay discursos responsables y discursos irresponsables y para mí el suyo ha sido hoy irresponsable y sí ha tenido una falta de rigor

qué difícil es justificar que siendo el principal problema de la contaminación

no lo haya mencionado ni una sola vez en diez minutos es complicado es complicado

en segundo lugar yo he hablado de valores oms y además lo he dicho valores objetivo un objetivo es aquello que se pretende alcanzar

de los municipios vascos son el objetivo hay que seguir trabajando para que el cumplimiento sea el cien por ciento valor objetivo lo he dicho al inicio

y señor otero y también señor becerra uno puede subir el nivel de exigencia hasta donde quiera

vino la transferencia en el ochenta y uno y a día de hoy tenemos cincuenta y cuatro estaciones fijas y le voy a decir tenemos una de las mejores redes

que denuncien y una vez de que lo hacen

no podemos dejarlas desamparadas no podemos decirles que sigan adelante sin ninguna ayuda y no podemos hacer un trabajo

yo he tenido la oportunidad de estar con el hermano de maguette y el hermano de maguette me preguntaba pero cómo es posible que nadie

quién es el responsable de esto a quién le tengo que pedir yo responsabilidades porque ha ido al juzgado y la juez ha dicho que no había motivos suficientes para dar una orden yo he venido más veces aquí y hemos puesto más denuncias y la ertzaintza tampoco nos ha acompañado ahora qué hago yo

no sabía qué contestarle no sabía que decirle porque efectivamente demuestra que a pesar de lo que décimos y de lo que hacemos a veces

eta niretzako ez da nahiko orain juan luis ibarrak esaten duenean la justicia ha fallado ya pero el problema no es que falle

la consecuencia es muy importante y sobre todo no tiene vuelta atrás cuando un órgano judicial dice que no le da una orden

o a cualquier persona que sufra violencia machista lo que hace es crear una especie de manto de impunidad en relación con el agresor eta gainera

sartu nintzen web orri batean en la del consejo del poder judicial eta hor ikusi nuen

el consejo les dice a los jueces cuando se denuncian cosas que parecen pequeñas que son cosas pequeñas que son delitos leves que son insultos que son

violencias graves porque eso muchas veces es la consecuencia después es una agresión mucho más fuerte y les dice que lo tengan en cuenta

eso no es así orain toki guztietan

es verdad y hay que reconocerlo y ponerlo además en valor

ha conseguido con mucho esfuerzo y mucho trabajo variar las conciencias ha conseguido además incluir la erradicación de la violencia machista en todas las agendas está en la agenda de todos y de todas nosotras y nunca ha habido tantas leyes tantos protocolos y tantas actuaciones desde todas las instituciones en relación con la violencia machista sin embargo

que a pesar de ello todavía sigue habiendo desfases que hay desfases en la aplicación de las leyes y que eso

hay una cuestión que es importante de señalar la violencia contra las mujeres la violencia machista la violencia contra todas las personas que la sufren

y así está reconocido en naciones unidas y en todas las cartas internacionales se vulnera un derecho fundamental cuando se hacen estas actuaciones y eso también queremos dejarlo claro por eso es necesario actuar por eso es necesario

akordioa neurri batzuk aurrera eramateko me parece muy importante este acuerdo porque demuestra y quiero decirlo también que esta cámara planta cara y se pone las pilas en relación con esta cuestión y que en esto por lo menos

en esto estamos todas y todos de acuerdo y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto cambie y este cambio sea posible

gauza desberdinak la pulsera que era uno de los puntos

vino a hablar lo que nos explicó es que se las ponen a las mujeres y que a ella eso le parecía una doble victimización porque es ella la que está controlada y lo que nos planteaba es que

entendía ella que tenía que ser en relación con el agresor por eso la propuesta recoge lo que ella nos decía y hemos llegado al consenso de que efectivamente eso sea así

planteamos revisar los protocolos también planteamos que

es importante las mujeres nos tenemos que empoderar tenemos que alzar la voz tenemos que transformar tenemos que hacer todas estas cosas

y para conseguir la igualdad real pero a veces solas no podemos necesitamos la ayuda de las instituciones y esa ayuda tiene que ser eficaz tiene que ser rápida

que situaciones como las que hemos visto estos días se vuelvan a dar que ninguna se quede nunca atrás que no vuelva a pasar esto es lo que queremos pero mientras tanto
vamos a poner en práctica e implementar las medidas que hemos acordado besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

bai eguerdi on guztioi para elkarrekin podemos la prevención y erradicación de las violencias machistas es un eje de trabajo prioritario

llegamos a esta legislatura las políticas feministas son una prioridad para este grupo parlamentario y tenemos el firme propósito de que las políticas feministas sean también prioridad de la agenda legislativa y de gobierno y eso se traduce en medidas concretas y recursos reales y suficientes

en el parlamento la desigualdad las violencias la discriminación en definitiva las vulneraciones de derechos de las mujeres

un obstáculo para alcanzar una sociedad plenamente democrática justa e igualitaria y es por eso que nos sentimos muy orgullosas en la transacción de esta iniciativa que además de incluir a las víctimas de violencia machista recogidas en la ley también se ha conseguido que por ejemplo en el trabajo de revisión de los protocolos así como

también de las niñas de las adolescentes e hijos e hijas de mujeres víctimas de violencias machistas en lo que vamos de dos mil dieciocho y al igual que en dos mil diecisiete continúan aumentando el número de denuncias por violencias machistas así lo afirman desde el consejo general del poder judicial el departamento de seguridad y la fiscalía

creciente número de graves episodios de violencia hacia las mujeres con consecuencias irreversibles en algunos casos hablamos de maría josé de cuarenta y tres años

y también hablamos de sus hijas e hijos de sus familiares de sus amistades de sus vecinas personas que se han quedado huérfanas por culpa de las violencias machistas

y también ha crecido el número de denuncias por violencia ejercida por desconocidos como por ejemplo las agresiones sexuales que se producen durante las fiestas de nuestros pueblos y ciudades el aumento de estas denuncias tiene una explicación que tiene que ver con una mayor conciencia social

es no en este caso y solo en este celebramos todo este aumento de denuncias reconocemos todos los avances logrados que se los debemos principalmente a toda la historia de luchas reivindicaciones y propuestas de las organizaciones de mujeres

y solo a través de su lucha se ha conseguido concienciar a los gobiernos y también

reconocemos que algunas políticas han sido importantes para sensibilizar y visibilizar pero echamos de menos una intervención muchísimo más valiente e integral que asegure sí o sí una prevención empezando por las escuelas hoy se ha rechazado aquí el debate por una escuela más inclusiva e igualitaria

poco se va a trabajar en la prevención como decía necesitamos una intervención integral que asegure además de la prevención también la detección precoz la atención

todas las instituciones a todos los niveles se comprometan y asignen recursos y si hablamos de recursos considera este gobierno que catorce euros por persona y año en los más de doscientos cincuenta ayuntamientos tres diputaciones y gobierno vasco son suficientes para nosotras no queremos una euskadi libre de violencia machistas y estamos convencidas de que la mejor estrategia para la prevención de las violencias

en absolutamente todos los ámbitos de la vida ante el aumento constante

ante los gravísimos episodios de violencias machistas de los últimos días

que una revisión crítica y responsable de lo que se viene haciendo más y mejores políticas sectoriales y transversales

de todo el gobierno vasco y por eso porque hay que hacer una revisión crítica

hemos registrado una iniciativa para que en una comisión cerrada por respeto a las víctimas las instituciones involucradas todas hagan una valoración de los sistemas de respuesta y aunque la iniciativa de hoy es un paso es cierto que es algo parcial y por eso nosotras propusimos esa evaluación a puerta cerrada de todos los sistemas existentes con la

que eligen denunciar en la comisión de trabajo y justicia tuvimos la oportunidad

escuchar el testimonio de la compareciente ziortza

por su generosidad y valentía para venir a compartir al parlamento su caso personal teniendo en cuenta su situación fue un acto enorme de compromiso

las mujeres y especialmente con aquellas que viven una situación similar a la suya a partir de su testimonio y del diálogo con expertas organizaciones de mujeres y el movimiento feminista sacamos algunas conclusiones con las que realizamos el trabajo

con la que pudimos repensar nuevas líneas de acción política todo esto

aportar a través de la enmienda que hicimos a la totalidad voy a compartir las principales ideas la necesidad de visibilizar que las violencias machistas no son solo golpes que hay múltiples formas de violencias machistas ejercidas por parejas

o desconocidos y que se deben asumir con la misma responsabilidad por parte de todas las instituciones que intervienen las violencias machistas son una vulneración sistemática y reiterativa de los derechos humanos y supone un obstáculo para el ejercicio de la ciudadanía

además de poner en riesgo la integridad física y sicológica impactan en la posibilidad de acceso y mantenimiento por ejemplo de un empleo en la posibilidad de participar en actividades

en la posibilidad de participar de tener una red comunitaria y social de disfrutar del ocio de la cultura en definitiva con violencias machistas la mitad de la población no puede ejercer no podemos ejercer plenamente nuestra ciudadanía no hay convivencia democrática ni justicia social

entendemos que las políticas de prevención y sensibilización son fundamentales pero la administración pública tiene que estar preparada también para atender para proteger y para reparar queda muchísimo camino por recorrer en estas áreas y no vemos los recursos necesarios para dar un salto cuantitativo ni cualitativo ámbitos recordemos el gobierno vasco destina un bajísimo cero coma once por ciento de los recursos para igualdad y erradicación de las violencias machistas recordemos una vez más que en euskadi en los más de doscientos cincuenta ayuntamientos tres diputaciones forales y gobierno vasco

para trabajar la igualdad y en consecuencia la erradicación de las violencias machistas lo hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos haciendo catorce

para erradicar las violencias machistas nos parece poco y cuando hablamos de transversalidad en los presupuestos señorías sin medidas concretas ni programas de evaluación para comprobar que esa supuesta transversalidad

no nos vale nuestro grupo viene trabajando en diferentes iniciativas para que los recursos aumenten aprovecho para instar a todas las formaciones políticas para que sean conscientes del problema de una vez por todas y pongan los recursos suficientes

más ninguna agresión más ninguna vulneración de derechos más las niñas y niños y adolescentes que viven situaciones de violencias machistas en el hogar son víctimas y como tales tienen que ser atendidas y deben ser protegidas en todos los servicios en todas las comisarías y en todos los juzgados con actuaciones adaptadas a la edad y los derechos específicos que les asisten como menores de edad necesitamos cambios en las políticas de erradicación de las violencias machistas

es una realidad que tenemos que revisar con autocritica y responsabilidad y modificar a la brevedad tendremos la comisión a puerta cerrada para poder trabajar todas estas

políticas y valorar si están funcionando o no las mujeres tienen que poder avanzar hacia un proyecto

y reparación que no revictimicen y condicionen lo menos posible su vida cotidiana

por ejemplo hemos entendido muy claro que la vigilancia veinticuatro horas

policial o judicial es muy importante pero no debería ser la única vía para acceder a toda la batería de medidas para la atención protección y reparación tendríamos que rediseñar otros itinerarios posibles para aquellas mujeres que informan de la situación en el sistema de servicios sistema de salud o sistema educativo y que no quieren o no están preparadas para una intervención policial o judicial voy terminando cuando hay que acudir al uso de

realizar desde administración pública un análisis responsable de todo lo que ha fallado anteriormente y no seguir poniendo pulseras sin haber revisado qué es lo que está fallando estos recursos además deberían ser la ultimísima opción y en la actualidad cincuenta y dos mujeres

no quiero acabar la intervención sin recordar que todas estas medidas que hemos aprobado en esa transacción deben de ser consensuadas y trabajadas organización con la participación de organizaciones de mujeres y feministas expertas en la materia y muy especialmente con la participación

que han sido víctimas y sobrevivientes de violencias machistas besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana andrea

egun on guztioi hoy nuevamente en el pleno

eh bildu y que en otra ocasión hemos traído otros grupos no porque siempre hay iniciativas y es interesante y lo habéis dicho de forma previa a mí

es necesario continuar hablando del problema de la violencia de género pero yo quiero poner en valor lo ha hecho jone y también eukene de alguna medida

en este parlamento el tema de violencia machista conseguimos

todas las fuerzas políticas porque yo creo que en este asunto en esta materia es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia yo creo que eso es un valor importante hoy en día en la política en esta materia en concreto tenemos en común y es que los objetivos que compartimos y que nos permiten acordar son muy claros para todas las formaciones políticas por un lado lograr la igualdad plena y por otro lado garantizar una protección y una intención una atención integral a las víctimas de violencia machista porque la violencia ya lo habéis dicho que en sus diferentes formas ejerce contra las mujeres atenta gravemente contra su dignidad

una violación grave de los derechos humanos una violencia que hunde sus raíces en la situación estructural de desigualdad que sufren las mujeres en los diferentes

a todas y a todos y hemos de reconocer

y lo hemos hecho en la dirección correcta no podemos dar otro mensaje diferente porque lo que antes se consideraba un asunto particular algo de lo que pasaba dentro ha pasado ya a ser un asunto público algo que concierne a toda la sociedad a todos y a todas y sabemos y sabemos y reconocemos

hay que dejar un mensaje claro y es que si sufres violencia tienes que denunciarlo que acudas a cualquier institución porque estamos para ayudarte estamos para acompañarte porque estamos a tu lado y hemos de insistir una y otra vez en este mensaje no comparto que

en el que hay que revisar desde esa posición crítica sí que se da el primer paso para reconocer sí desde la responsabilidad pero para avanzar

o de esos agujeros que en este momento tiene el sistema sabemos y compartimos que la violencia de género hay que abordarla desde políticas de igualdad plena

puedan desarrollar sus capacidades y tomar sus decisiones sin limitaciones impuestas por estereotipos y sabemos y compartimos que las políticas públicas deben ir encaminadas

la violencia de género y tenemos que trabajar sin descanso para lograr esa igualdad real pero también debemos trabajar

y buscan en quienes les representamos la protección suficiente y es verdad

pero también es verdad y lo reconozco que es un sistema que no es perfecto que tiene agujeros que tiene disfunciones porque lo que se nos trasladó por ziortza no fue que no tuvo un sistema al que acudir nos habló de determinadas disfunciones de determinados agujeros habló de la atención psicológica de lo que costó

fundamentalmente a sus hijos nos habló de que tenía justicia gratuita y que lo agradecía porque eso le había permitido una defensa pero que

abogados que le fueran atendiendo en los diferentes incidentes porque no había

y eso les limitaba a los compañeros a los abogados que iban compañeros de profesión quería decir a poder atender bien su situación

y pudiera contarnos porque encontró una referencia en el acompañamiento y

necesario para ella en ese momento en ese acompañamiento como digo yo íntimo terapéutico en el servicio de atención a la víctima bueno es verdad que nos contó también

de esa falta de credibilidad que le daban agentes u operadores a los que se tenía que dirigir esos comentarios inadecuados de la ertzaintza que le atendió esa falta de credibilidad o esa

pero eso es lo que tenemos que intentar mejorar y creo que eso es a lo que hemos intentado o a lo que le vamos a dar propuestas en nuestra

la necesidad de que euskadi cuente con una ley específica para la erradicación de la violencia contra las mujeres pero estamos en este momento

ver la mejor manera de abordarlo lo que más le preocupa a mi grupo y a mí es que la técnica más que la técnica legislativa que empleemos es que seamos capaces de consensuar

eficaz que sea transversal y eficaz y esa eficacia y lo ha dicho también eukene tiene que ver fundamentalmente con la coordinación con la formación

con la no revictimización nosotros queremos hablar de una ventanilla única para atender a estas mujeres y lo que queremos es que estas mujeres que acaban de ser agredidas o que sienten miedo o que deciden en un momento llamar a una puerta sea cual sea

tengan acceso a la atención sanitaria de vivienda policial o de cualquier otro tipo que precisen que realmente

y la iniciativa a pesar del título que se le dio inicialmente que hablaba del control telemático en casos de violencia machista lo que coloquialmente conocemos como las pulseras y de las que

a través del testimonio valiente que nos hizo ziortza y que tenemos que agradecerle pues tiene una visión

y es en esa amplitud de perspectivas de ámbitos de actuación de agentes concernidos en la que hemos logrado transaccionar una enmienda por todos los grupos políticos y que también el partido popular va a apoyar aunque no la ha podido firmar porque no presentó en su momento una y aunque habéis explicado algunas de las medidas yo creo que es importante que desde la tribuna digamos una y otra vez

refiriendo porque todos los grupos y también el socialista creemos que es necesario que todos los departamentos concernidos del gobierno vasco el de seguridad el de justicia el de empleo el de vivienda el de educación el de servicios sociales coordinados a través de emakunde revisen los protocolos de actuación porque tienen que corregir las disfunciones que se están poniendo de manifiesto y esto se tiene que hacer fundamental también en colaboración

asociaciones de mujeres y asociaciones de víctimas de violencia porque ellas son las que conocen de primera mano qué es lo que está fallando con qué obstáculos se encuentran y es imprescindible también que el gobierno de españa mejore

las famosas pulseras para que cumplan con el objetivo para el que estaban diseñadas y es que la víctima esté protegida que se sienta segura que se puedan certificar los incumplimientos los quebrantamientos y no la angustia y el medio

también el consejo general tiene que implicarse y debe fomentar que la judicatura utilice estos medios de control y que se forme realmente en igualdad las instituciones vascas gobierno vasco diputaciones forales y ayuntamientos han de incidir dentro del acuerdo interinstitucional de atención a las mujeres víctimas de género para que se mejoren los servicios destinados a la ayuda integral de estas víctimas y también ratificamos tal y como hemos hecho los socialistas y otros grupos en el pacto de estado contra la violencia

se apliquen sobre el victimario si así lo solicita la víctima es decir que sea el agresor el que tenga que soportar ese control y no la víctima

deja de permitirte una vida ordinaria y en último término también pedimos y eso lo comparto lo ha explicado muy bien jone que el colegio de la abogacía y de la procuraduría deben de

del abogado de oficio en el turno especial que tenemos de violencia de género de tal forma que un solo letrado y un procurador atienda todos los incidentes judiciales desde el inicio hasta el final de una víctima yo creo que es importante

volvamos a recalcar el esfuerzo que hemos hecho por mantener la unidad de voz y de acción en ese sentido siempre tenemos que dejar cuestiones que a todos nos gustarían fuera tenemos voluntad compartimos el objetivo se han dotado recursos se tienen que seguir dotando

queremos plantar cara al problema no queremos que ninguna se quede atrás hacemos propuestas así que vamos a por ellas muchas gracias eskerrik asko castelo andrea

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos efectivamente nosotros no habíamos presentado enmienda y no la habíamos presentado porque a pesar de ser usted abogada señora goirizelaia y que nos hayan acusado de tener palabrería

pedía cosas concretas y determinadas estábamos de acuerdo con ella porque además partía efectivamente de una comparecencia que se hizo en la comisión y estábamos de acuerdo con lo que allí se planteaba hablar

que casi todo está dicho pero yo sí quisiera decir algunos datos porque aunque es verdad que los datos a veces puedan parecer fríos detrás de esos datos siempre

un menor o una menor cuya vida ha sido truncada por esta lacra que

dos mil trece en el caso de los menores que es cuando se empezaron a recoger datos sobre víctimas de violencia machista novecientos cuarenta y tres mujeres y niños han sido asesinados

casos de asesinatos de mujeres y ocho de menores en lo que va de dos mil dieciocho treinta y ocho mujeres han sido víctimas de violencia machista en el conjunto de españa en ese año dos mil diecisiete

por ciento más que el año anterior y con relación a las órdenes de protección

en euskadi dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas en el año dos mil diecisiete y la semana pasada lamentablemente comenzábamos este pleno

y en el dos mil diecisiete con un aumento perdón del ocho coma tres por ciento en el dos mil diecisiete con relación al dos mil dieciséis y las órdenes de protección incoadas en los juzgados vascos

casi un nueve por ciento un ocho coma noventa y ocho por ciento siendo un total

dos mil diecisiete en el caso de la última víctima tal y como

una orden de alejamiento que le fue denegada se reconoció por parte de la justicia por parte del señor ibarra que la justicia había fallado y es bueno el reconocimiento

para que se puedan tomar medidas para cambiar esos fallos para evitar que vuelva a suceder y eso pasa

como se ha dicho aquí por la prevención por la puesta en marcha de medidas preventivas y por la educación fundamentalmente y también pasa por denunciar porque lo que hay que dejar claro es que es necesaria la denuncia que sigue siendo necesario

porque cuáles son las razones que pueden llevar a una mujer a no denunciar pues el miedo la dependencia económica y la falta de autoestima suelen ocupar los primeros puestos de estas razones

que cuando se pone una denuncia lo que se emprende es un calvario en vez de una liberación de una situación de maltrato y esto es lo que no puede suceder

puede suceder que es que cuando una mujer se decide a denunciar se encuentre con que no se le ofrecen las suficientes garantías por ello es necesario tomar medidas tal y como decía la iniciativa que lo que hace es recoger lo que aquí ziortza linares

que es que ella decía que no hubiera iniciado todo el procedimiento

todo el proceso todo el calvario por el que tenía que pasar y esa afirmación

no hubiera denunciado eso sí es un fracaso eso es un fracaso del sistema es un fracaso de todos porque todos instituciones profesionales asociaciones medios de comunicación instamos a las mujeres a que no se callen a que rompan el silencio a que denuncien

muy importante la denuncia pero es duro escuchar las palabras de una mujer que vivía el calvario que estaba viviendo ziortza y escucharle decir

denunciado y que ello hubiera supuesto que continuaba en esa situación de maltrato tampoco se trata de repartir culpas de ver quién ha fracasado más de quién es la responsabilidad porque yo creo como decía antes que es un fracaso de todos que es fracaso

que por tanto entre todos entre todas las instituciones entre todos los agentes tenemos que poner los medios para evitar situaciones de maltrato y para que en el caso de que se produzcan la actuación sea integral desde el primer momento que se sienta atendida protegida y acompañada

establecían en la iniciativa una serie de medidas con las que estábamos de acuerdo con relación a la recepción de las denuncias en cuanto

y también con relación a las medidas cautelares que es una de las cuestiones que han salido aquí que nos llamó la atención en la comparecencia

es importante la adopción de esas medidas es importante la valoración

en alguna medida ya se está planteando incluso algunas de esas medidas ponerlas a riesgos

a riesgos altos y es importante la imposición de las medidas y es importante la vigilancia del cumplimiento de dichas medidas y la reacción ante cualquier incumplimiento de las mismas porque solo daré un dato pero según el último informe del observatorio de género del consejo general del poder judicial durante dos mil diecisiete se produjeron cerca de quince mil quinientos quebrantamientos de medidas

son altos en los casos de malos tratos pero no existe un registro y creo que eso también debiera ser algo a plantearlos y una de las cuestiones que han salido aquí es el fallo de los medios de control

ha habido otras referencias no solo en euskadi sino también fuera de euskadi de esos fallos que es que en ocasiones pitan a menudo y no siempre pitan por la existencia

porque no se recargan porque no hay cobertura en ese momento por múltiples razones y esos continuos pitidos hacen que las víctimas acaben estresadas y que en muchos casos pues les lleve a poder rechazar el sistema

va a renovar todos los dispositivos tal y como se exigía en el pliego redactado por el gobierno y tras esa renovación los equipos que estaban

sustituidos por otros hirug aunque también es verdad que muchos de

personas implicadas en esta protección ya dicen que probablemente ese sistema tampoco sea perfecto

todos sus elementos también se plantea la iniciativa que además de estas medidas de control

la víctima que sea el agresor y también se ha dicho aquí el que tenga que soportar esas medidas

es necesario realizar una serie de cambios legales estamos

los agresores como decía los que tengan al final que soportar

se le produce una segunda victimización y con que en su caso

que sean necesarias también estábamos de acuerdo con lo

punto sobre esa atención integral y esas mesas de coordinación

esa atención como digo integral desde el primer momento se solicita que por parte de los colegios de abogados y procuradores se haga un único nombramiento para todos los procedimientos yo creo que en alguna ocasión se ha intentado creo que tiene complicación pero bueno en cualquier caso

que se sienten desde el gobierno vasco con los colegios de abogados y procuradores y en la medida que ello

para finalizar diré que nosotros estábamos de acuerdo con la iniciativa original que finalmente se ha llegado a una enmienda a través de un consenso y nosotros vamos

en este tema quizás uno en los que más importante es y que como bien se ha dicho aquí generalmente se consigue y un consenso también

era precisamente eso que las mujeres que sus hijos y sus hijas estuviesen protegidas en todo momento incluso desde que su médico de cabecera identificase el más mínimo indicio de maltrato entre las doscientos trece medidas que allí se establecían

protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario de formación del profesorado

y había veintiséis medidas concretas que por falta de tiempo no las voy a decir para este dos mil dieciocho que algunas de esas medidas precisamente algunas se han implementado otras se van a implementar y van en la dirección

de la propuesta original y de la transacción a la que finalmente

como se ha dicho aquí se dan pasos es cierto que todas las instituciones están implicadas que todos los agentes estamos implicados las asociaciones pero que queda mucho por hacer y que

un granito más un paso más para intentar como digo que situaciones como la que tuvimos que condenar aquí en el pleno